consejeros consejeras señorías bien con brevedad puesto que

eminentemente técnico hace cinco años se actualizó el código

mundial antidopaje y bueno tarde o temprano tenía que llegar este texto

pasada legislatura lógicamente no se pudo aprobar este proyecto de ley y lo que es una cuestión técnica que es a la adecuación la armonización

a la conferencia mundial antidopaje que dio como resultado un nuevo código mundial antidopaje

es lo que se hace es acomodar nuestra legislación a la legislación internacional yo creo que nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas de

fueron la mayoría de las enmiendas fueron asumidas en el texto

con el propio texto de clarificación de concreción algunas de técnica legislativa estrictamente pero los principios fundamentales estaban no en el texto del gobierno vasco

internacional a todos los niveles niveles estatales niveles autonómicos en este caso de esa necesidad es decir vuelvo a decir que eso es lo relevante y que ya se debía haber aprobado pero bueno estamos en ello y lo estamos haciendo ahora

por esa cuestión técnica y calidad técnica de este proyecto de ley nos opusimos también a la enmienda de totalidad que se presentó por parte de elkarrekin podemos

con este proyecto de ley código internacional antidopaje armonización adecuación qué se pretende ello en relación con el control y la neutralización de las prácticas

mayor seguridad jurídica fundamentalmente eso se consigue con cuestiones que tiene que ver con la tipificación de las infracciones en materia

sean analizadas por determinados laboratorios

sanciones incrementándose de forma sustancial periodos de suspensión

fundamentalmente que inciden en el control en la neutralización de las prácticas

de dopaje eso fundamentalmente viendo que en este mundo deportivo las cuestiones que afectan al dopaje

tenemos que tener una legislación y una normativa que se adecue permanentemente a la neutralización del dopaje del doping en el deporte

por eso mismo ha sido relativamente fácil buscar un espíritu constructivo o un acuerdo con

como lo ha hecho la administración deportiva del estado e internacional y entendemos que

fundamentalmente no eran aceptables porque distorsionaban de alguna manera los criterios y el sentido del planteamiento exigido por ese código mundial antidopaje para esta cuestión innecesariamente algunas cuestiones o desviaban la atención innecesariamente sobre las cuestiones y desde luego ese planteamiento esa mención que ha hecho la señora ubera al ámbito competencial cuando no tiene ningún sentido porque ha formado parte

y acomodación a criterios absolutamente de consenso y de necesidad así que no hay ningún problema desde luego señora ubera en relación con cuestiones competenciales usted ha querido traer

tratar cuestiones de autogobierno y competenciales

si tiene que manifestar sus reservas desde luego es mejor que incida

los que acertamos somos los que adecuamos la legislación una legislación también nueva una ley del dos mil doce

una cuestión inminentemente técnica votaremos en contra de las enmiendas de bildu y a favor del proyecto de ley muchas gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días a todas y a todos sí volvemos a hablar del proyecto de ley

la posición que ha mantenido el grupo socialista desde la presentación del proyecto

en esta legislatura en la fase de enmiendas de ponencia en el dictamen en la comisión y ahora creemos que esta ley era oportuna y era necesaria

que la adaptación al código mundial antidopaje del dos mil quince que es fundamentalmente a lo que viene destinado el proyecto de modificación de la ley al margen de introducir la creación de la agencia vasca antidopaje que refuerza si cabe aún más el objetivo y la voluntad del fin

contra esta práctica del dopaje en el deporte pues nos ratifica aún más euskadi yo creo que desde hace tiempo ha venido ajustándose y ejerciendo sus competencias en esta materia desde el principio primero con modificaciones en la ley

la modificación de esa ley vasca del deporte que es por sobre todo casi tan urgente como esta

caso también se ha querido ejercer esas competencias para favorecer el interés y el interés común

contra el dopaje en el deporte finalmente

para el deporte en muchos casos en el debate

las enmiendas la verdad que con la creación de la agencia mundial

decidió establecer unas normas comunes una actuación conjunta para todos los estados y organizaciones para todas las instituciones públicas y privadas creemos que la forma de funcionar contra esta práctica que no funciona en un territorio sino

conjunta por eso creemos que la adaptación y quedarse en el marco de sanciones

mundial antidopaje y esas modificaciones del dos mil quince es lo que da garantía de eficacia de eficiencia en todo el ámbito en el que se produzcan estas prácticas que insisto no se limitan al territorio de nuestro país sino que tienen una proyección

mucho más internacional porque simplemente la redes

las redes delictivas y las organizaciones que son las que suministran todos estos productos no funcionan en un único territorio

a nivel global igual que lo hace el propio deporte y la actividad deportiva

de la comisión y por las razones que he expuesto insisto y lo vuelvo a decir yo no creo que en este proyecto de ley haya más cosas que nos diferencien que las que nos unen al revés

no creo que haya diferencias en la oportunidad de traer la ley no creo que haya diferencias

y las diferencias en el contenido que efectivamente puede haberlas son prácticamente invisibles es verdad que sí se han mantenido

global o fundamental de la ley que es el régimen de infracciones y sanciones pero insisto yo creo que son prácticamente

de la cámara eso sí también tengo que reconocer que es mejor el que sale

fundamentales para el grupo socialista que se han aceptado vía enmienda y que han sido gracias

a la aportación de la señora ubera y el grupo eh bildu en dos temas que a mí me parecen prioritarios que es la perspectiva

la mejora la visión y la garantía de la perspectiva de género que informaba toda la ley y lo mismo ha ocurrido con el respeto y garantía de los derechos lingüísticos estaba pero se ha reforzado también por lo tanto en esas dos cuestiones yo sí creo que el texto es mejor de como entró por eso digo que el contenido es para consensuar que me gustaría

prácticamente no visibles pudiera salir por unanimidad en esta cámara porque creo que es en el fondo lo que compartimos

al menos por el mensaje que podemos dar no tuviera ningún botón contra muchas gracias a todas y a todos eskerrik asko romero

eta gero ba aitzakiatzat hartu guk daukagula que si socio preferente que si negociaciones

euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza sí sí con su permiso desde el escaño lo cierto es que la señora ubera parece

tanto conflictivo en la pasada legislatura ahora se haya arreglado a través de los acuerdos normales que hacen las administraciones y que venga aquí con un

lo que era la administración vasca y en ese sentido conformando la modificación que las organizaciones internacionales antidopaje establecen o sea eso es increíble ya que la crítica sea porque se ha llegado a acuerdo

había que meter la cuña competencial o la cuña de autogobierno aunque sea en contra del sentido común

en la comisión pero en cualquier caso vuelvo a decir es una ley que tenemos que aprobar ya porque se tiene que poner en marcha ya la agencia vasca antidopaje los elementos que tratan de están esperando que esta normativa

alto grado de consenso que podamos pero efectivamente yo creo que la reflexión de podemos y de eh bildu tiene que venir en un sentido positivo y no

sí gracias señora presidenta si me permite desde el escaño únicamente

el que está saliendo yo creo que finalmente el que este parlamento aprueba la modificación de la ley antidopaje conforme a los estándares

la mayoría de instituciones con las competencias que tengan y las organizaciones privadas y públicas positivo la actuación conjunta y compartida en base a unos mismos parámetros para nosotras da garantía de eficacia y eficiencia y eso es una buena noticia
para la práctica deportiva y para la lucha contra el dopaje y era el único mensaje que quería dejar gracias eskerrik asko

buenos días a todas las parlamentarias como ya se ha comprobado

la modificación de ley ha sido aprobada y nosotras desde el principio presentamos una enmienda a la totalidad porque hemos expresado a lo largo de este proceso desde nuestras intervenciones

comparecencias y en el debate queríamos recalcar y lo hemos hecho la importancia de este documento y lo necesaria que nos parecía la revisión de la ley contra el dopaje y de esta manera valoramos muy positivamente la adaptación y la actualización de esta iniciativa al marco internacional y al código mundial antidopaje si bien

por algunos agentes del sector desde hace tiempo en opinión de nuestro grupo deja puntos claves sin desarrollar y sin adaptarse de forma íntegra y completa

contra el dopaje en el deporte en todos sus ámbitos por ello presentamos

que nos parece insuficiente para elkarrekin podemos este proyecto adolece de algunas carencias que ya hemos enumerado en otras ocasiones y

o la tarjeta deportista porque bajo nuestro punto de vista

que se debería integrar también nos parecía fundamental la creación

claros cuyo contenido buscar a la concienciación ciudadana en todos los niveles y que se desarrollaran actividades en eso programas informativas formativas divulgativas de sensibilización así como de prevención en materia de salud y dopaje además

en este proyecto es la ausencia de referencias en un apartado claro y definido al doping animal este tipo de doping también es deplorable

debería estar perseguido y contemplado en esta ley ya lo hemos

en euskadi competiciones en las que existe el doping animal

esta situación hay otra medida que

que tiene que ver con un registro antidopaje público y consultable respetando por supuesto la protección de datos además nosotras entendemos que se debería negar cualquier subvención o ayuda a toda entidad deportiva o deportista que haya sido sancionado por infligir la normativa antidopaje

para elkarrekin podemos se debería reclamar también cualquier ayuda pública recibida en el texto que se ha aprobado como ya han comentado otras portavoces

se habla del cambio en las infracciones y a nosotras nos parece que sería necesario introducir cambios en las sanciones económicas a deportistas a los clubs y a las entidades deportivas

considerablemente porque para nosotras uno de los objetivos fundamentales de la lucha antidopaje

de deportistas que sea sana feliz y que compita en igualdad de condiciones en definitiva desde elkarrekin podemos valoramos que la propuesta normativa del gobierno y la que ha sido aprobada es insuficiente y no recoge todas las realidades y necesidades del sector tenemos que ser innovadoras y contundentes

y por eso hoy nos hemos abstenido si queremos que el deporte y la actividad física sean parte de la vida diaria de todas las personas que viven en euskadi

no podemos promover las trampas y tenemos que fomentar un ejercicio de la actividad física

inclusivo y ético con nosotras mismas y con los animales y sobre todo formar a las personas más jóvenes de nuestra sociedad porque entendemos que la igualdad de condiciones es fundamental en la formación y el desarrollo de las diferentes competiciones mila esker

relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales

del impacto relativa a la protección de datos lo siguiente cuando sea probable que un tipo de tratamiento en particular se utilizan nuevas tecnologías por su naturaleza alcance

el responsable del tratamiento realizará antes una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales

acerca del reconocimiento de este derecho diciendo que la normativa y la jurisprudencia reconocer por favor que no me oigo ni pensar

de otros tradicionalmente reconocidos como el derecho a la intimidad o el derecho al honor porque este el derecho a la protección de datos

e impone importante a los terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera privada de la vida de la persona por lo tanto

que el derecho a la protección de datos tiene como propósito evitar el tratamiento ilícito y lesivo para la dignidad y los derechos y libertades de la persona interesada también dice la señora ortiz que la sentencia del tribunal constitucional doscientos noventa y nueve barra dos mil

en materia de protección de datos porque deja en manos de la administración muchas cuestiones que de facto hacen que las personas afectadas no puedan acceder ni rectificar ni cancelar la información que sobre ella sobre todas nosotras

de la administración pública y eso señoras y señores genera indefensión al conjunto de la población si a esta indefensión de la normativa se la combina con el desconocimiento y la poca conciencia que la ciudadanía tenemos sobre el derecho la protección de datos tenemos un caldo de cultivo preocupante es por ello que nos atrevemos a afirmar en esta tribuna que lo que hace lanbide con la huella digital es un abuso

pone en riesgo la capacidad de las personas de ejercer su derecho fundamental

y yo entiendo que además debemos analizarlo desde distintas perspectivas en primer lugar desde el ámbito de lo ético donde estoy segura que no vamos a tener un acuerdo porque lo ético en este caso

y para nosotras no es ético lo que se está haciendo a día de hoy en segundo lugar desde la perspectiva de lo procedimental es decir en cómo se aplican las medidas a la luz de la información que tenemos ahora mismo sobre la mesa y en relación con el procedimiento de implementación

aquí y tal vez desde mi ser ilusa entiendo que podemos y debemos coincidir porque la ley se cumple o no se cumple

de todas nosotras no cumpla con la ley en este punto y solo

no obstante quiero ampliar un par de elementos porque creo que es importante que describamos el porqué

de ponerla en un lugar tan importante desde el plano ético no vamos a andar con engaños o medias verdades saben ustedes sabemos todas que nuestro grupo no está de acuerdo con la implementación de la huella digital como elemento de identificación obligatorio ni en lanbide ni en el garaje de esta casa

no estamos de acuerdo con implementar medidas de control de estas características para el ejercicio de derechos porque son desproporcionadas y además en este caso porque solo se aplican a un sector de la ciudadanía que son las personas con mayores dificultades para ejercer derecho

porque no consideramos que sea necesario en la línea con lo que establece el reglamento europeo nos parece un mecanismo agresivo nos parece un mecanismo poco proporcional al fin que persigue

respecto de la importancia que tiene pero es que además en elkarrekin podemos no estamos de acuerdo porque entendemos que implementar esto en un servicio es consolidar

día a día con sus discursos e incluso con campañas institucionales sobre miles de personas que están en una situación vulnerable pero sobre todo porque es hacer experimentos con cuestiones muy delicadas y con personas con las que hay que comportarse con

con más y mejor responsabilidad de lo que se está haciendo a día de hoy desde un punto de vista ético también en elkarrekin podemos no podemos decir sino que es indignante

por qué no empezar por otros ámbitos por qué elegir a las personas desempleadas a las personas pensionistas a las personas en situación de pobreza a las vulnerables y a las que van a generar en definitivas una menor oposición a una medida como esta

por qué no empezar por otros departamentos lo que pasa es que a nadie se le ocurre pensar en que no te dejen ir al médico por no poner tu huella digital o no te dejen hacer la declaración de la renta por no poner

y esto pues señoras y señores a nosotras no nos parece ético no es ético y el mensaje que se traslada a la ciudadanía desde este gobierno de la responsabilidad

o mejor dicho me van a encontrar al frente a nuestro entender también porque no cumple con la ley no se cumple a día de hoy con las recomendaciones

europeo pero es que además siempre desde un punto de vista ético es imposible que en el marco de lanbide y de los sistemas en general tanto de empleo como de prestaciones condicionadas se garantice que el consentimiento se haya dado de manera libre

cuando tu capacidad para comer o dar de comer a tu familia depende de poner o no

libremente desde un plano procedimental señoras y señores también

y no es propio ni oportuno ni desde luego tolerable en un gobierno serio desde el diecinueve de marzo se está aplicando la medida de la huella en diez oficinas

tienen un objetivo de llegar al menos a treinta huellas por día tirando por un cálculo más bien bajo

identificadas sin regulación sin solventar la inseguridad jurídica sin tener información y sin tener garantía de que su consentimiento

en la comparecencia de la agencia vasca de protección de datos en esta casa se dijo claramente

y que la idea de establecer la obligatoriedad no pareciera respetar la normativa en materia de protección de datos pero el gobierno y lanbide cual burro con orejeras

y siguen adelante manifestando expresiones como que la huella será obligatoria o que se va a llevar hasta las últimas consecuencias es una pena

sobre todo y respecto al procedimiento decía la señora uria máxima representante de la agencia vasca de protección de datos que la evaluación del impacto y el análisis de riesgos son exigencias no recomendaciones sin embargo como ya decía más de diez mil personas están identificadas a día de hoy

pero no solo en la instrucción aprobada por la dirección de servicios generales de lanbide que me han enviado como respuesta a una pregunta de elkarrekin podemos hay mucha miga

por decir que estamos hablando y denunciando la medida de identificación biométrica pero es que resulta que la parte que no cuentan es que lanbide está exigiendo además de la toma de las diez huellas digitales el reconocimiento facial sí por si no lo sabían

de reconocimiento facial se toman más medidas en lanbide cárcel reconocimiento facial que por si no lo saben también les indico que hay muchas personas expertas que la ponen en cuestión

muy poco fiable que ha generado ya muchos problemas en su aplicación y que no se reconoce como medida validada de identificación pero aquí lanbide la aplica todo vale

en esta misma instrucción encontramos varias contradicciones al inicio se matiza que la implementación de la huella en este programa piloto es voluntaria pero al describir los procedimientos se indica una y otra vez al menos en siete ocasiones que resulta obligatoria asistimos a un espacio de discrecionalidad que entendemos que además de ser contrario a ley y reglamento es injusto y absolutamente improcedente dicen textual

y eso además de no estar aprobado en ninguna ley a día de hoy en el reglamento europeo de protección de datos concretamente en su artículo cuarenta y tres se establece que hay que garantizar que el consentimiento se haya dado libremente y para ello no debe haber

de los datos y lo dice porque entiende que es improbable que ante una administración pública el consentimiento se haya dado libremente de nuevo nada de nada de lo que hace

y señores esto se implanta y listo y se condiciona o se pretende condicionar el acceso a un derecho si no se dan las huellas o el reconocimiento pero es que además no hay ni una sola mención en toda la instrucción a lo que tiene que ver con informar a la ciudadanía acerca de sus derechos acerca de sus riesgos y acerca de lo que supone dar tus datos a través de la huella digital ni una sola cómo se va a garantizar con este procedimiento que el consentimiento

explíquenmelo podría pasarme los quince minutos destripando esta instrucción pero sí que quiero

porque nos parece muy grave una obligación que este gobierno se saca de la manga cosa que a lanbide le gusta muchísimo dice cuando se habla de incidencias en el registro

se le comunicará la obligación de disponer de un teléfono de contacto y de una dirección

voy simplemente a traer aquí unas palabras del anterior ararteko el señor lamarca sobre la einclusión decía que el posicionamiento de las personas en una u otra fase del empoderamiento digital

de uso de apropiación y de participación nosotras décimos que todas esas cuatro brechas son también brechas sociales y se están dando en el organismo que debería proteger a la ciudadanía la ciudadanía que tiene competencias más o menos limitadas no tiene desde luego ninguna obligación

precaria y que tal vez no puede pagárselo y para ir terminando y respecto al ámbito estrictamente legal el meollo de la cuestión que hoy tenemos que abordar volvemos

cuestión que insisto son exigencias legales el grupo de trabajo del artículo veintinueve

decía que el uso de la huella como mecanismo de identificación puede conducir a una disminución gradual de los derechos de la ciudadanía

si el mismo fin puede lograrse por un medio menos invasivo que solo podrá utilizarse para proteger un interés público importante y que nunca podrá tener lugar sin el consentimiento

y explícita decía también que corresponde al legislador

ley para establecer la base jurídica en el tratamiento de los datos y especialmente en el caso de las categorías especiales categorías que recuerdo ocupan el debate

seguimos sin tener nada y parece que en el debate de hoy no vamos a tener nada este es nuestro posicionamiento diáfano desde este lugar y en un ejercicio de responsabilidad presentamos una moción de mínimos una moción que exige que se cumpla la ley

es de sabias y en su moción en la que partido socialista de euskadi y partido nacionalista vasco reconocen que es necesario cumplir con determinados trámites legales

se cumple nosotras presentamos los pasos lógicos y esto no va a salir adelante no va a salir adelante con la vulneración de los derechos de nuestra ciudadanía

obligatorio y lo mínimo saben que la evaluación del impacto la normativa específica es poner luz y taquígrafos a algo que no se está haciendo bien luz y taquígrafos sobre un derecho fundamental amenazado

de este país por lo que dice la ley pero sobre todo porque no se pueden implementar medidas de este tipo así a lo loco aunque a veces en la obsesión de ser policía de la pobreza

honetan teniendo en cuenta que ya debatimos sobre la implantación de la huella

este grupo el grupo popular desde luego considera que en la implantación de una medida que nosotros consideramos positiva de cara a mejorar la gestión de lanbide y

el partido popular ya trajo una iniciativa para la implantación de este mecanismo de identificación en lanbide y tengo que decir que la iniciativa tal cual pues fue votada en contra y se llegó a una transacción que

en lanbide en la administración pública también en general a la que luego me referiré la implantación

como un medio de identificación en los servicios vascos de empleo

mejora sin duda la gestión en lanbide permite este sistema acreditar la identidad de las personas de una forma rápida eficiente y segura y además no podemos ser ajenos a la incorporación también de las nuevas tecnologías

como decía permite acreditar de una forma más efectiva la identidad de las personas el reconocimiento biométrico

digital mediante datos biométricos y a parte todos tenemos que recordar

es una de las obligaciones de toda administración pública es decir verificar exactamente que la persona usuaria es la que dice que es

la realización de actuaciones en el ámbito administrativo como decía nosotros presentamos una iniciativa la pasada legislatura concretamente se debatió el trece de abril de dos mil quince y era una muy sencilla y muy concreta y muy clara

que se iniciaran los mecanismos necesarios para implantar la huella digital en lanbide como sistema de reconocimiento de los usuarios

con el objeto de mejorar el servicio pero esta iniciativa no fuera tenida en cuenta y por lo tanto salió otra transacción que como digo

y hablaba más de modernizar y actualizar los sistemas de identificación digital pero no hablaba de la implantación de la huella digital que era la iniciativa que planteo este

encontramos con una de las propuestas cuando la consejera la señora artolazabal presenta en la comisión correspondiente propuestas de modernización y mejorara de la gestión de lanbide pues nos encontramos

eso sí también la señora consejera se preocupó de explicar y

que quería implantar o poner en marcha el partido popular lo cierto es que después de

de prácticamente dos años de legislatura no tenemos esta medida implantada y nosotros desde luego consideramos

absolutamente necesaria para mejorar la gestión y el control en lanbide que creemos que es una de las cuestiones absolutamente imprescindibles

de este gobierno de mejorar la gestión en lanbide pero también es cierto que las dos herramientas fundamentales que se tenía intención por parte de este gobierno

poner en marcha todavía

tengo que recordar que este gobierno renuncia a presentar el proyecto de ley de modificación de la rgi

que le apoyan al partido socialista y al partido nacionalista vasco

legislativa todavía no ha comenzado en el parlamento vasco y también otra de las reformas de lanbide

aunque sí se ha remitido a los grupos pues no se ha producido también el debate monográfico que en su momento

este plan de mejora de lanbide por lo tanto nosotros entendemos que se está dilatando la implantación de esta medida y de todas maneras también

vemos la previsión que contempla la implantación de esta medida

al gobierno vemos que esta ley además va a entrar en vigor

de su publicación en el boe es decir puede acabar la legislatura viendo los plazos que se alargue la tramitación de la normativa más que un año no va a entrar la ley en vigor hasta un año después pues obviamente

la realidad de la implantación de la huella digital como medio de identificación en lanbide

lo vemos con bastante preocupación vemos que este gobierno está demorando la implantación de la

servicio vasco de empleo nos preocupa indudablemente que este tema se esté alargando en el tiempo

que es una medida necesaria para nosotros para mejorar la gestión y el control en lanbide y además

encima garantías de que se vaya a implantar de forma definitiva vemos que esa dilatación pues a ver a qué nos lleva y no vemos una voluntad real a pesar de los anuncios que obviamente han ido detrás de la demanda social detrás de las propuestas que ya puso encima de la mesa el partido popular en la pasada legislatura

por parte de este gobierno en implantar esta medida me voy a referir a las iniciativas presentadas obviamente

de podemos porque busca paralizar claramente la puesta en marcha de los proyectos piloto que están en marcha y al respecto tengo que decir

para respuesta escrita a ver si había incidencias qué tipo de incidencias había habido tras la fase piloto y se nos contestó que no había habido ningún tipo

la implantación de esta medida por otra parte creo que la enmienda presentada por el partido socialista y el partido nacionalista vasco

bueno en principio yo creo que pretendía transar o llegar a algún tipo de acuerdo con la iniciativa original

no hablen de la implantación de esta medida y no hayan metido un párrafo de apoyo a esta medida a la medida de la

cosa que sí tengo que decir que lo ha hecho el partido popular en la que instamos al gobierno a que simplemente

de lanbide de forma total y definitiva es decir creemos que este es un proceso que no se puede parar creemos que es un proceso que no se puede alargar y creemos que haber voluntad real de este gobierno de implantar esta medida que sin duda va a mejorar en los servicios de lanbide y por otra parte y ya acabo señora presidenta sí que creemos como también compartimos con la señora guanche

con las garantías absolutas en materia de derechos de los ciudadanos en materia de intimidad de privacidad en este sentido

a que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las previsiones legales

en ese sentido creo que no hay un acuerdo pero nosotros nos mantendremos en nuestra iniciativa original que lo que persigue es que se implante el método de identificación de la huella digital con las garantías necesarias y

la nueva normativa europea en vigor nada más muchas gracias eskerrik asko

sí gracias presidenta hoy debatimos en este punto sobre la toma de huellas a personas desempleadas para acceder

y en concreto sobre la implementación en los servicios de lanbide en la actualidad se está llevando a cabo una experiencia piloto

antes de terminar el uso definitivo o no de la misma con fecha veinticinco de mayo ha entrado en vigor el reglamento europeo relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos dentro de la cual se considera categoría especial de datos entre otros

por medios biométricos como huella digital también la ley quince barra mil novecientos noventa y nueve de protección de datos de carácter personal

biométricos como indica también el propio nombre de la ley tienen carácter de consideración

de carácter personal hace poco con fecha quince de marzo de este año compareció en este parlamento la directora de la agencia vasca de protección de datos

de su uso como mecanismo de identificación debiendo de tener que contar

explícito y no tácito tras una previa información a las personas que vayan a autorizar su uso y debiendo de haber garantías suficientes de que ese consentimiento es realmente libre

señalan que este tipo de categorías especiales necesitan una especial regulación pudiendo utilizarse dicha identificación de la persona

en estos momentos se está tramitando en el congreso de los diputados un proyecto de ley orgánica de protección de datos con el fin de actualizar el ordenamiento jurídico español

de estos para tener en cuenta esta cuestión se consideró necesario que dentro del texto de la proposición de ley sobre la reforma de la renta de garantía de ingresos se recogiera en la disposición adicional

la modificación del apartado tres del artículo dos de la ley tres de trece de octubre de dos mil once sobre lanbide servicio vasco de empleo que queda redactada

a confusión asimismo lanbide servicio vasco de empleo tiene como finalidad la modernización del sistema de atención a las personas usuarias de sus servicios y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en la comunicación

de empleo utilizará sistemas biométricos para la identificación de las personas

atendiendo a las especificaciones derivadas de la legislación de protección queda claramente recogido dentro de la misma como no podría ser de otra manera que su uso deberá de hacerse atendiendo siempre a las especificaciones derivadas de la legislación de la protección de datos el decreto siete barra dos mil dieciocho de diez

de la comunidad autónoma vasca atribuye al departamento de gobernanza pública y autogobierno la figura del delegado de protección de datos y deberá existir también una persona responsable de esta área dentro lanbide vinculada

datos del gobierno vasco según manifestó en el pleno de esta cámara el veinticinco de mayo pasado la propia consejera de empleo y políticas sociales la señora

donde se debatió la interpelación de la moción que hoy nos ocupa también la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas

se hace referencia a la implementación de la administración electrónica

con la finalidad de facilitar procedimientos más ágiles simplificados y transparentes de los ciudadanos en su relación con las diferentes administraciones

se da importancia a la necesidad de llevar a cabo una correcta identificación de los ciudadanos y también a la obligación que recae en las administraciones

de las personas interesadas ante sus actuaciones en el procedimiento administrativo a seguir ante la misma habilitando para ello sistemas lo más rápidos simples y seguros posibles de identificación de dichas personas es por ello que últimamente el uso de los sistemas biométricos han cobrado una gran relevancia en los entornos donde se requiere la identificación de las personas usuarias de servicios en múltiples campos

permite la identificación de las mismas tomando como base un conjunto de datos reconocibles y verificables que son únicos para dicha persona y que disminuye mucho las posibilidades de confusión en la identificación de dicho usuario pero desde luego y aunque es positivo

que se busquen procedimientos cada vez más avanzados y seguros de identificación de las personas en el ejercicio de sus derechos y de sus relaciones con la administración ello deberá de ir acompañado

adecuado de la necesidad de dar unos pasos previos para que se garantice también los derechos de los ciudadanos en todo momento en esas relaciones por eso

a la totalidad la enmienda presentada conjuntamente entre nacionalistas vascos y socialistas vascos donde se señalaba en primer lugar y se instaba por parte de este parlamento al gobierno vasco a presentar

biométricos en esta cámara dando cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos

por lo que antes de iniciar su uso definitivo se debe de contar con el mismo y es por ello por lo que lo metíamos en nuestra enmienda a la totalidad

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a impulsar la elaboración de un protocolo específico para la implementación de medidas de identificación biométricas

consideramos que la realización de este protocolo tiene especial importancia y es bueno contar con el mismo antes de adaptar la decisión de su uso

y en tercer lugar insta al gobierno a que la agencia vasca de protección de datos emita un informe sobre el cumplimiento

de protección de datos en el gobierno vasco tal como manifestó la directora de la agencia de protección de datos en su comparecencia este informe es relevante

el consenso lo más amplio posible tanto con el pp con el grupo elkarrekin podemos no podíamos con el grupo eh bildu dado que no han presentado enmienda a la totalidad en esta iniciativa

no ha sido posible no importa tenemos tiempo de debatir espero sobre esto y sobre muchas cosas más

se inicia con la proposición de ley de reforma de la renta de garantía de ingresos y para la inclusión que se ha iniciado entre este parlamento y que hemos presentado conjuntamente los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos

que en el mismo todos trabajemos en la búsqueda de dicho consenso del máximo consenso

y mejorar nuestro sistema de garantía de ingresos en beneficio de todos los ciudadanos en esta tarea siempre hemos estado mi grupo parlamentario siempre hemos estado y estaremos los socialistas vascos

honela baitio con el fin de contribuir a que la iniciativa de implementar

me parece un paso adelante el hecho de asumir que la identificación por medio de la huella dactilar se va a poner en marcha y que parece que con su iniciativa lo que buscaba era mejorar o que se pudiera hacer con garantías me parecía bien que

en su justificación ni tampoco lo utilizó en su discurso el día de la interpelación y además esa estigmatización de colectivos

cuando son de especial sensibilidad a los que usted hoy sí que ha hecho mención aquí porque desde luego dicha estigmatización no se da en ningún caso y por lo tanto a nosotros nos parece imprescindible que la desterremos de nuestros discursos pero de verdad señora guanche que después de haberle oído en la tribuna tanto el tono

pues me dejan mucho que pensar yo pensaba que habíamos avanzado un poco usted hablaba de mínimos pero en su discurso en su tono en su creo no sé si a eso se le puede llamar avanzar quedarnos donde estamos o incluso

no me ha parecido responsable por lo menos en aras de buscar ese acuerdo para intentar mejorar si es lo que usted

respecto a la ley treinta y nueve barra dos mil quince de uno de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas profundiza en la implantación de la administración electrónica

esos procedimientos según la ley han de dar respuestas a las necesidades actuales de la sociedad y redundar en una necesaria simplificación administrativa para la ciudadanía estamos convencidos que este modo de identificación va encaminado a ello

en orden a verificar la personalidad de las personas interesadas para que estas puedan válidamente realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo la captación de datos biométricos es una de las formas más eficaces y ágiles para identificar a las personas la identificación

adecuada a la tecnología actual y que agiliza toda la tramitación que se vaya a realizar en este caso con lanbide a nuestro juicio ello redundará en la mejora y seguridad del servicio finalidad que estoy segura

la utilización de fórmulas de gestión digitales y telemáticas hacen que los servicios prestados por la administración sean más eficientes y ágiles

a que se den respuestas de forma más rápida y adecuada utilizando para ello estas nuevas fórmulas de relación y de iniciativas telemáticas insistimos en que ello redundará en la mejora del servicio prestado a la ciudadanía

a día de hoy se procede a identificar de forma voluntaria mediante la huella dactilar a personas que acuden a lanbide siempre

en varias oficinas de lanbide donde se ha implementado como plan piloto la nueva forma de gestión de lanbide encaminada también a la mejora de los servicios y prestaciones que facilita como estamos plenamente convencidos de la mejora que supone esta nueva forma de gestión

que es importante continuar con los planes piloto y con la huella dactilar como forma de identificación voluntaria por eso señora garrido no

porque no estamos de acuerdo en paralizar dicha medida que nos parece una forma ágil moderna de identificación y que creemos que además es segura y evidentemente que los datos serán tratados de la forma pertinente porque son datos de especial protección en eso

para poder aplicar la identificación por medio de la huella dactilar a todas las personas que se relacionan con lanbide es necesaria su regulación mediante disposición legal cuestión ya prevista en la ley de modificación de la rgi presentada por los grupos que sustentamos al gobierno y así se aprobará la disposición que dé cobertura legal a su implementación previamente a establecer este medio de identificación de forma generalizada respecto a la iniciativa original compartimos varios de sus puntos rechazando como ya le decía

piloto en las que se identifica las personas usuarias insisto de forma voluntaria mediante las huellas dactilares porque no existe

paralizar dicha manera de identificación y además porque creemos que se mezcla el establecimiento

nuevo modelo de gestión de las oficinas de lanbide con

importante en aras a buscar esa mejor gestión y esa mayor eficacia el que la gestión

y se pueda ir adecuando a las necesidades y los defectos o cosas mejorables se puedan ir haciendo para que insisto

de la ciudadanía tampoco creemos que sea necesaria

una normativa específica que regule esta forma de identificación solo lo entrecomillo

pero no debe ser necesariamente por medio de una ley específica y concreta solamente para lanbide y compartíamos en esencia lo planteado

creíamos que el origen o lo que buscaba con su iniciativa era que se dieran todas las garantías necesarias para poderlo establecer de forma generalizada y por eso creíamos que podríamos llegar a un acuerdo y es cierto que la enmienda que presentamos el grupo socialista y el partido nacionalista vasco iba

para poder llegar a un acuerdo pero bueno no ha sido posible como decía al principio seguiremos hablando seguramente

de la huella dactilar y de los datos biométricos y que sepan que nosotros siempre estaremos dispuestos a intentar llegar a acuerdos pero creemos que también
el tono y la voluntad también se demuestra con los discursos que realizamos besterik ez mila esker eskerrik asko

para que se me entienda y el servicio de traducción no tenga ningún problema este tema se puede abordar desde dos perspectivas bien distintas una es la perspectiva de una cuestión de gestión de modernización de la administración pública

aséptico y totalmente neutro y hay otro punto de vista que es el punto de vista

de los derechos humanos y de la estigmatización de la pobreza que es de lo que hoy quiero hablar

ni quiero hablar de paro quiero hablar de estigmatización y criminalización de la pobreza

y lo quiero hacer empezando por algo que normalmente no me suele gustar hacer pero que como es algo público y creo que viene a cuento sería interesante

con algo personal bueno yo lo confieso yo fui perceptora de la rgi

como todos ustedes conocen porque fue algo que fue publicado en distintos medios de comunicación en el dos mil once yo tenía veintitantos años era autóctona de esas de las que han nacido siempre aquí y resulta que tenía un despacho de abogados en el que sí sí no no es así y tenía un despacho de abogados que era recién comenzaba y claro como todos ustedes saben cuando un negocio comienza

tenía una hija a la que alimentar porque tenía una pareja en prisión o una hija a la que alimentar en solitario por lo tanto era madre soltera a todos los efectos

y existe una ley que me permitía solicitar esa ayuda

esa ayuda se me concedió porque reunía todos los requisitos que establecía la ley y esa ayuda yo fui informando a la diputación a través de la trabajadora social que era como se hacía antes de pasar al sistema al sistema de lanbide y bueno yo iba informando a través de iva trimestrales etcétera es cierto también que era profesora de la upv pero he de decir que los profesores de la upv cobran cuatrocientos cincuenta euros

se hagan una idea de cuál es la situación de la upv que será tema de otro debate

las revisiones que hacía la diputación las hacía de manera tardía y esas revisiones se conceptualizaron en una palabra

que si la utilizáramos en las declaraciones de la renta

se llevaría las manos a la cabeza un concepto como prestaciones indebidas que luego fue un bombazo cuando todo el tema pasó a lanbide y se descubrió que había muchísimas prestaciones indebidas qué sucedió con esta palabra bueno sucedió también que me llegó esa carta en agosto justo cuando la ciudadanía

este sistema el control la gestión y la modernización de este sistema entonces llegó en agosto pasó al boletín porque evidentemente en agosto yo no estaba y en cuanto pasó al boletín algún periodista carroñero decidió hacer de eso una bola gigante y se puso la sombra

yo era presuntamente defraudadora de la renta básica y por tanto de las ayudas de emergencia social que también me correspondían decidí explicar esta cuestión y desde aquí quisiera agradecer al entonces juntero markel olano del partido nacionalista vasco y al juntero del partido popular iñigo manrique la ayuda personal que me prestaron y el no haber caído en el carroñerismo político como lo hizo algún otro

que no es de los que he mencionado vale entonces vista la presunción de culpabilidad que tuve vista la presunción de culpabilidad que tuve por haber sido receptora de ayudas de renta básica y de ayudas de emergencia social ahora veo y me imagino a las señoras divorciadas que pasan por mi despacho y que necesitan complementar sus pensiones compensatorias por ejemplo

sus trámites administrativos pasar allí y tener que ser fichados como pobres y la verdad es que me produce auténtico estupor y yo creo que estamos hablando de eso y no de otra cosa recuerdo a un juez que bueno que una vez un rico fue condenado en una sentencia

pero que tampoco voy a mencionar dijo que era una pena porque no era delincuente como si delincuente fueran solo algunas personas y no ricos que cometían delitos que esos también deberían ser delincuentes no pues pasa un poco más o menos lo mismo estamos hablamos como si fuera algo inocuo y no lo es no es inocuo

porque la huella dactilar solo se va a aplicar en la modernización de lanbide oye

de toda la administración vasca sería interesante podría ser un tema independientemente con sus brechas de seguridad habría que ver cómo se produce el tema de consentimiento informado etcétera no pero casualmente se nos ocurre hacerlo en lanbide

porque todos sabemos que no es inocuo hacerlo para ir al polideportivo o para meternos en el garaje de este parlamento que hacerlo para recibir una ayuda

para renovar los trámites administrativos de parados de larga duración y voy a poner otro ejemplo por ejemplo el brazalete de un organizador de una carrera ciclista eso es algo inocuo era algo inocuo el señalamiento a los judíos en la época nazi pues no es lo mismo no es lo mismo y creo que no se puede comparar

una frivolidad ya lo dice el reglamento aprobado en mayo por la unión europea lo dice claramente los datos biométricos necesitan más seguridad más cautelas éticas más cautelas tecnológicas y más cautelas en cuanto a garantías de información y garantías de la gestión de esa información porque es otro ámbito muy importante

aquello era un tema porque entonces sí la protección de datos era muy importante algo en lo que estoy totalmente de acuerdo pero tan importante es en la gestión de la fiscalidad como en la gestión de lanbide porque cuál es el objetivo el objetivo real que tiene el departamento cuál es la modernización y la agilización pues vamos a agilizarlo en las multas de tráfico o en osakidetza vamos a generalizarlo vamos a hacer un planteamiento general de modernización de la administración pública

porque yo creo que cuando la primera rueda de prensa que se hizo la primera exposición pública que se hizo el planteamiento no era la modernización de la administración este fue un argumento que vino después venía en un paquete antifraude antifraude un paquete antifraude que como bien sabemos el fraude en la rgi es de un uno por ciento

el fraude es siempre importante y hay que controlarlo y hay que perseguirlo da igual si ese fraude se comete

a nivel fiscal el fraude siempre será fraude y eh bildu siempre estará en contra del fraude y siempre estará a favor de mecanismos de control

es decir que haya un sistema de control de fraude legitima el propio sistema de rgi

son perceptores legalmente reconocidos porque se han hecho las suficientes cribas y los suficientes mecanismos de control para que efectivamente sean merecedores de eso ha habido otro cambio también al principio la señora artolazabal planteaba

ha tenido que venir la agencia vasca de protección de datos a decir que obligatoria no puede ser que ese sistema es lo suficientemente invasivo y lo suficientemente dudoso éticamente

con la seguridad y las nuevas tecnologías pero debemos tener en cuenta que

y que esas brechas de seguridad fallan a menudo independientemente de que se establezcan sistemas antibrechas fallan a menudo y sabemos

cuando el sistema es biométrico el fallo no tiene retorno no es lo mismo y el ejemplo que nos puso

o que se ponga el sistema de la huella dactilar que no se puede restablecer eso no tiene reparación posible

con respecto al consentimiento informado que solicitaba la agencia de datos yo creo que es un tema muy importante el consentimiento informado primero la información tenemos garantías de que esa información se da en condiciones hay una información unificada hay una información formada

de la administración de lanbide lo dudo y ese consentimiento es libre

tiene que recibir las lentejas después de hacerlo es un consentimiento que se da de manera libre

decir por un lado que un sistema una sociedad se puede organizar en función de la desconfianza en función de la seguridad y el control o se puede organizar de una manera en la que

y cohesiona esa ciudadanía y yo creo que este elemento no es ni cohesionador ni protector de la ciudadanía es más bien al contrario insistir en que no estamos desdeñando el fraude ni en la rgi ni en ningún otro

que sí que tiene que haber un control pero que el control

ahí es donde tenemos el elemento entre la política y la ética tenemos que tener una concordancia y en este caso no está justificado éticamente la aplicación de esa medida no está justificado ni por los objetivos que tiene ni por los costes de los que no hemos hablado pero los costes que supone este sistema

desde un punto de vista ético deberíamos echar para atrás el freno

se dice que estamos en fase piloto pero en una fase piloto que ya está implementada entiendo que no hay prisa mucho menos si algo es voluntario si es voluntario por qué tanta prisa

si algo fuera obligatorio sí yo creo que la señora artolazabal sigue planteando que esto va a ser obligatorio y yo creo que tiene la esperanza que cuando la ley se apruebe esto vaya a ser obligatorio

no es capaz de hacerlo eskerrik asko ugarte

eskerrik asko mahaiburu andrea antes de empezar a responder una por una

al principio no he sido clara en esta moción que presentamos no hay oposición por oposición y desde luego no hay una actitud ludista de querer acabar con la tecnología no es eso ni de lejos lo que hay es querer que las cuestiones

que es nuestra responsabilidad se apliquen con garantías legales porque a día de hoy

y se apliquen también con accesibilidad porque la administración de garantizar que los derechos de la ciudadanía son accesibles y esto a día de hoy tampoco se cumple la sensación con la que me quedo y es algo que me da

es de que aquí los partidos que sustentan al gobierno les guste más o menos admitirlo les duela más o menos admitirlo se han comprado el discurso del señor maroto y ese discurso

ni permite respetar a las personas ese discurso es racismo es aporofobia y es criminalización

es lo importante el señor maroto hablaba de la huella para

que las nuevas tecnologías son indispensables para la mejora de los servicios públicos nosotras no nos oponemos a la mejora de los servicios públicos cómo

pero desde luego sí nos oponemos a que se apliquen sin las garantías legales y como una obligación porque eso no se ajusta a la ley señora garrido

la iniciativa porque eso nos indica que sí que vamos en la buena dirección

de impunidad sobre los derechos fundamentales de las personas usuarias de lanbide y no sé

señora sánchez la ley no se cumple cuando se pueda y la proposición de ley aún no está aprobada si no hay garantías se paraliza y ya está porque rectificar es de sabias y la moción que les hemos puesto sobre la mesa era una moción para que nadie tuviera que perder por el camino

si nos lo puede aclarar yo le agradecería porque en todo esto desde luego hay muchas cosas que no son claras me parece

necesarios por qué no lo han hechos antes está en sus manos en sus manos señora artolazabal está haberlo hecho antes y ustedes

con una actitud que nos permita a todas poner algo y no solo dejar pelos en la gatera a la oposición señora arregi

el tono no modifica el contenido y disculpe usted sí mi tono se altera cuando estoy preocupada

debo estar ocupada además de preocupada usted afirma que damos pasos adelante yo en mi discurso creo que he sido clara

primero del lugar que ocupamos y luego también somos conscientes del nivel de simpatía que esto despierta tanto en ustedes como en las señoras y señores del partido popular

asumiendo el lugar que ocupamos y los posicionamientos que hay en esta cámara asumimos que estoy va a ir para adelante pero asumimos que va a ir para adelante

jurídicas y sin respeto a los derechos fundamentales de la población eso nunca lo vamos a asumir han dicho usted en su discurso

que habrá cobertura legal pero lo ha formulado usted en futuro está reconociendo que a día de hoy

la ley no se cumple y esto es una tónica general de lanbide y esto es algo intolerable podemos debatir sobre sí la huella va a ser más eficaz o más ágil el sistema de lanbide discusión en que no se puede implementar así y en que no puede ser obligatoria en eso no hay discusión señora ugarte eskerrik asko me parece usted muy valiente por compartir este discurso porque es una muestra clara

que opera en lanbide que operaba cuando usted era perceptora y que sigue operando a día de hoy y que me temo que con esta actitud seguirá operando por más tiempo

esa necesidad de consenso se ponga en el centro y pensemos entre todas cómo hacer las cosas mejor estoy totalmente de acuerdo en que lo que subyace a todo esto es el discurso de la criminalización y les planteo simplemente que se piensen por un segundo qué pasaría si ustedes van a pedir una cita a osakidetza y les dicen no oiga para tener una cita en osakidetza primero tiene usted obligación de tener un correo electrónico segundo tiene usted que darme la huella digital no no es que yo no quiero dar la huella digital ah es que entonces no va a poder ir al médico porque eso es lo que de facto está pasando se pretende que pase en un futuro no muy lejano porque ustedes están dando por hecho la aprobación de algo que dicho sea de paso no está todavía aprobado y no debería señora artolazabal estarse

yo creo que con un tema importante como es este no se debería de dramatizar y creo que por parte de algunas personas intervinientes en esta tribuna ha habido cierto dramatismo yo

y de bildu porque obviamente son dos grupos que se han mostrado en contra de esta

nacionalista vasco en contra de esta medida la pasada legislatura y de hecho votó en contra en el dos mil quince una iniciativa

que hablaba de la implantación de la huella digital como medio de identificación

de lanbide por eso yo también en mi primera intervención he querido recalcar que este gobierno va tarde que tampoco tenemos garantías de que esta medida realmente se implante de forma definitiva puesto que está recogida en una previsión en la proposición de ley presentada por los grupos nacionalistas vascos y socialistas en relación a la modificación de la

la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social y teniendo en cuenta que además en otra disposición se habla claramente de que entrará en vigor

que esta medida absolutamente necesaria segura efectiva con garantías

de lanbide que era el propósito del partido popular ya hace tres años cosa a la que se negó este gobierno y parece ser

con lanbide le ha superado la realidad de los hechos la realidad de los datos la realidad social la preocupación social y al final es un gobierno que se ha visto en la necesidad

de traer aquí su propio proyecto de ley en relación a la modificación de la ley para la garantía de ingresos

los grupos que le apoyan el que haya traído esta iniciativa en cualquier caso señora guanche sí le tengo que decir que nosotros estaremos con usted cuando no se cumpla la ley o sea ahí no tenga ninguna duda nos encontrará podrá buscar nuestro apoyo nosotros buscaremos el suyo cuando veamos actuaciones

y este gobierno no cumple con la legalidad creo que no se puede quedar la actividad de los grupos de la oposición en una mera

pertinentes en cualquier caso también tengo que decir que veo y por eso me refería al dramatismo

a la situación personal y a la descripción de algunas situación personal como no podía ser de otra forma

cuando el anterior debate ustedes hablaban de un pasaporte genético para los deportistas es decir estamos hablando de un control

de las personas usuarias de la administración pública cuando la obligación de las administraciones públicas precisamente es verificar la identidad de las personas usuarias

alguna prestación como es el caso cuando ustedes plantean en sus propuestas a la iniciativa

al principio de esta sesión parlamentaria nos hablan de un pasaporte genético de los deportistas anda que si no hay control en los datos genéricos de una persona y qué tratamientos se le puede dar

a esos datos y anda que no tiene que haber garantías

datos y bueno voy acabando con los partidos que apoyan al gobierno el partido nacionalista vasco y el partido socialista yo creo señora

en lanbide pues lo que tendrían que hacer realmente es apoyar la iniciativa del partido popular yo sí que y se lo he dicho en mi primera intervención me he quedado un poco sorprendida

con el grupo proponente porque de hecho reproducen alguno de su párrafos no así la paralización pero sí he echado de menos que si este gobierno apuesta ahora ya no sé si de forma decidida

de la iniciativa que es la implantación de la huella digital que propuso el partido popular en la pasada legislatura

ahora en estos momentos este gobierno está por la implantación de esta medida

más que votar la enmienda que ha presentado el partido popular besterik gabe

bueno señora guanche señora

dar la huella para nosotros creo que es lo mismo cuando se da y lo hemos hecho nosotros todos sus señorías se la acaban de pedir para poder meter el coche en el parking que para acceder a la renta de garantía de ingresos aquí se ha dicho alguien ha pensado en la ética y tal y cual yo aquí no he visto que nadie haya levantado la voz porque se ha pedido la huella para entrar

en el parking para poder entrar el coche todas sus señorías la han dado sin plantear ni media en ese caso pero sin embargo es como ultracatastrofista si se pide para otras cosas

ser los sistemas biométricos en lanbide creo que es una exageración

que pedir es que todo ese proceso se haga conforme marca la normativa en esa materia y que se tengan todas las garantías y yo creo que en eso

nos hemos centrado en el tema que estrictamente nos ocupa

de otros debates que no aportan nada y que han venido confundiendo a la ciudadanía respecto a la verdadera realidad de nuestro sistema de garantía de ingresos no creíamos oportuno y así se lo hice saber a usted el otro día señora guanche que este debate tuviera que venir con carácter previo a debatir dentro de este pleno la propuesta de ley que recientemente

socialista pero usted ha decidido traerlo hoy a esta cámara hemos tenido un amplio consenso hasta ahora en esta cámara respecto a que se debe separar

de planteamientos xenófobos que se han dado en otros momentos

y que no corresponden con la realidad no insista ahora usted en esta línea porque nosotros desde luego no estamos ni hemos estado ni vamos a estar nunca

que procuremos conseguir ese consenso más amplio posible con el fin de modificar y con el fin de consolidar nuestro sistema de protección de garantía de ingresos y nosotros

con un buen sistema que ha servido de colchón para reducir la pobreza durante la larga crisis vivida queremos mejorarlo en beneficio de toda la ciudadanía vasca no estamos de acuerdo fundamentalmente y se lo dijimos a la hora de llegar la transacción en el punto ahora mismo se está realizando la experiencia piloto y se va a llevar a cabo el informe de valoración de resultados obtenidos en esa experiencia en breve no pasa nada no hemos llegado a un acuerdo no pasa nada seguiremos debatiendo sobre el tema

como he insistido hoy aquí le invito a que su grupo pueda seguir votando a favor de nuestra enmienda para que puedan salir aprobados que se recogen dentro de la enmienda a la totalidad que vamos a defender el grupo nacionalista vasco y socialistas vascos que creo que también son importantes señora garrido usted ha hecho referencia en su intervención que se debatió en la anterior

en las que ahora mismo estamos no tienen nada que ver con las circunstancias que se vivían en aquel momento que como he dicho el debate estaba centrado en un punto

nadie quiere poner el foco sino que estamos en otro momento completamente distinto y si verdaderamente tiene interés en mejorar el sistema de garantía

más amplio posible en la reforma de la renta de garantía de ingresos en la que

el sistema ha cambiado mucho afortunadamente desde que usted tuvo

con la renta de garantía de ingresos y estamos caminando en seguir trabajando en la mejora y consolidación de ese sistema de

los socialistas siempre hemos defendido además el cumplimiento de la ley lo hemos hecho siempre y como no podría ser de otra forma lo vamos a seguir

sistema desproporcionado fuera de toda ética nada responsable

yo creo que estaba describiendo su propio discurso desproporcionado fuera de toda ética o sea se ha permitido el lujo de hablar

creo no sí piense y lea bien lo que ha dicho me parece desde luego totalmente desproporcionado y fuera de lugar

usted de verdad sinceramente cree que hay impunidad en lanbide sí pues ya sabe que hay medios y métodos para

y se permite el lujo de decir en tribuna que no se está cumpliendo la ley cuando hay un incumplimiento legal cuando hay un incumplimiento legal existen unos procedimientos determinados para acudir a los tribunales cada uno iniciar las medidas que pertinentes desde luego nosotros el grupo euzko abertzaleak y ni el gobierno vasco asumimos

ninguna ley le hemos dicho que se está haciendo de forma voluntaria en este momento consentimiento informado aunque la señora

ponía dudas respecto a qué formación etcétera existía ha habido cursos de formación al respecto en lanbide en los sitios en los que se ha puesto en marcha de forma como piloto como plan piloto y se está haciendo de forma voluntaria insisto también ahí mencionaban las dos

no se empezaba por otros departamentos de la administración que esto suponía una vez más hablábamos de estigmatización de estigmatizar a la pobreza por utilizar las palabras sí estigmatización de la pobreza decía la señora ugarte pues nosotros

evidentemente porque y ahí está la diferencia con la iniciativa anterior señora garrido la de la legislatura anterior ustedes el señor maroto quería establecer esto

no estábamos de acuerdo y menos cuando estábamos a las puertas de unas elecciones y se lo dijimos que podríamos hablar de todo

estuviera lejos de un periodo electoral y de buscar un puñado de votos mediante iniciativas

nuestra voluntad se puede hablar absolutamente de todo y dentro de esa mejora de la gestión para que sea más ágil y eficaz

que lanbide pueda dar un mejor servicio está la medida

de poderse identificar mediante datos biométricos que se pueda empezar por otros departamentos

también lo estimen pertinente yo no veo ningún problema vamos pero

de empleo y políticas sociales lo pensó que era una forma más ágil y eficaz y así se hace no solamente para los perceptores de ayudas o de prestaciones y de servicios va a ser para todas las personas que se relacionen con lanbide sí señora guanche estoy yo en el uso de la palabra y así es

tan importante es en la fiscalidad como en lanbide la protección de datos por supuesto lo compartimos y usted también decía que

que están totalmente de acuerdo con todos los paquetes antifraude y que los apoyarán y que hay que perseguirlos siempre

estamos de acuerdo y a favor de mecanismos de control contra el fraude porque además legitiman el propio sistema asumimos y compartimos

lo que no estamos de acuerdo es en que este sistema o que esta medida se haya establecido solamente para montar todo el sistema bajo ese prisma o en función de una seguridad y un control y basada en una desconfianza nosotros eso

lo que creemos es que es una medida que mejorará y agilizará la identificación y que redundará en la mejora del servicio y

una sociedad más cohesionada y más protegida en aras al sistema de protección que tenemos que además hay una propuesta para debatir y para mejorarlo en función de lo que se vaya y las diferentes posturas y las diferentes aportaciones que hagan el resto de grupos besterik ez mila esker

lo cual significa que hay mucho que hacer para modernizar el sistema de lanbide mucho para modernizar el sistema

no estamos en parámetros de exquisitez y excelencia en esta materia hay muchísimo trabajo por hacer dice la señora garrido que alguien ha utilizado el dramatismo supongo que se refiere a mí

yo creo que sí creo que ha sido obvio y yo se lo voy a hacer más obvio creo que ustedes hablan de este tema con una frivolidad que a mí me asusta

yo entiendo que para ustedes es importante que la clase media vaya contra la pobreza porque a río revuelto

gana la clase alta eso es así y si no que se lo pregunten a maroto pero bueno eso todo sigue dentro de la línea lo que más me preocupa es que

se llevaba las manos a la cabeza y decía no no prestatarios de la rgi solo no y tal y ahora lo adjunten a parados

arduragabekeria galanta se habla de cumplir la ley y yo diría que es una ley que todavía está en elaboración todavía está en elaboración y por tanto no entiendo

luego se nos dice que va a ser voluntario primero se nos dice que es una medida antifraude luego se nos dice que no que no que es para modernizar la administración

en qué queda porque si el objetivo es el control y las medidas antifraude tal y como lo planteó la señora artolazabal en sus inicios

euskal herria bildu no va a estar ahí porque no está de acuerdo

la protección de la ciudadanía y buscar una sociedad más cohesionada que es lo que yo entiendo que deberíamos estar haciendo aquí y en el gobierno vasco entonces hay que esperar a lo que marque la ley hay que hacer toda la secuencia hay que hacer todo el debate y cuando se acabe esa secuencia política entonces podremos debatir también de este tema y ver cuáles son las garantías cuáles son las garantías para que la ciudadanía pueda tener relación se pueda relacionar con la administración no solo con lanbide lo vuelvo a decir porque claro

como si estuviera abierto al resto de opciones pero yo no he visto ninguna iniciativa por parte de ningún otro consejero o consejera en este sentido

con una connotación política muy concreta y con una connotación electoral también muy concreta y eso es lo que ha quedado hoy aquí en evidencia porque no veo ninguna otra iniciativa no veo que haya un impulso por parte del gobierno vasco de que la huella dactilar sea el futuro de la relación de la ciudadanía vasca porque toda la ciudadanía vasca podríamos tener una huella dactilar y con esa huella dactilar y la de la diputación porque además con todo el entramado institucional que tenemos

poder ir a hacienda hacer la declaración de la renta puedo pagar la multa de tráfico que es del gobierno vasco

etcétera pero no hay ningún planteamiento de esos encima de la mesa lo que hay es que aquellos que decía maroto que tenían que ser registrados y fichados como pobres se han adjuntando otros campos que también son pobres no reciben prestaciones pero también son pobres y luego

tan estigmatizador creo que estamos a tiempo de corregir esto y

bien como dije cuando se sustanció esta interpelación

a los cuatrocientos cincuenta alumnos y alumnas de primaria y los doscientos cincuenta de secundaria del colegio luis briñas

patrimonial su importancia arquitectónica fue diseñada por el arquitecto pedro ispizua

pero este valor que es importante y es importante para bilbao ha tenido un reverso y es que a nivel arquitectónico pues no se puede hacer en este colegio determinadas obras

a la estructura del edificio por eso cuando se quiso contar con un patio cubierto pues se tuvo que hacer efectivamente una

un patio cubierto que había sido largamente demandado por los profesores por los padres y las madres de este colegio porque el no tener precisamente un patio cubierto lo que les obligaba

pues lo que obligaba es que los días de lluvia tuvieran que estar dentro

bastante importante y yo lo pude como dije en la interpelación escuchar

así lo refleja por ello este grupo en el año dos mil trece y para los presupuesto del año dos mil catorce presentó una enmienda que resultó aprobada para que se hiciera en este colegio un patio cubierto bueno parece que no tenía nada que ver que eso estaba dentro de ese plan de infraestructuras

el otro día y en este pleno tuvimos ocasión de oír por boca de la señora consejera la verdad es que antes debiera de haberse hecho porque como digo

lo que se diseñó no fue un patio cubierto por mucho que aquí se dijera el otro día que

se diseñó una pista cubierta y de hecho el proyecto el proyecto así lo establece no habla de patio cubierto habla de pista

algo bien distinto y que además estoy convencida de que después cuando todas estas cuestiones pasen entonces sí se dirá que el gobierno vasco ha ido mucho más allá

se empeña en decir que es un patio cubierto bien

la consejería las obras se iniciaron el veintiuno de noviembre

en el propio colegio la comisión aterpe que era la que se encargaba del seguimiento

ya desde el comienzo de la obra y puesto que se les dijo a los propios

pues llamó la atención el que no tuviera vestuarios porque lo normal es que en una pista deportiva se puedan tener vestuarios y desde luego

la distancia que desde la pista cubierta hay hasta el baño más cercano porque yo lo pregunte y lo quiero dejar patente aquí los que

desde la pista de abajo hasta el primer baño y realmente es un camino largo que como dije si vas con prisa y los niños suelen dejarlo todo para última hora

pues se pierden o la clase o el descanso por eso se propuso en esta cámara el que se hiciera

se estaba ejecutando y no solamente por muy puntual que pueda parecer esta

de informe del ararteko porque se llevó el asunto al ararteko y parece como dice aquí que el gobierno vasco

bueno pues no nos hace caso a este parlamento pero tampoco parece que al ararteko le haga

peticiones porque se lo tuvo que pedir el ararteko varias veces al departamento el veintiocho de marzo se remite un informe pero cuando se remite ese informe ya estaba la verdad

en la que se viene a decir que la normativa administrativa no permitía realizar

con los baños y con los vestuarios para ver cuál era la ubicación más adecuada que viendo como es in situ el proyecto hombre la ubicación parece bastante clara pero bueno

y hay un refrán que dice castellano que es las cosas de palacio van despacio

porque de verdad que despacio vamos un rato el ritmo de ejecución de los proyectos de este gobierno pues ya se ve como en buckingham es necesario que pasen

incompleta por eso en la iniciativa y luego en la enmienda hemos puesto un plazo para que

de manera adecuada esa infraestructura pues

otros cuatro cinco o diez años para tener unos baños o para tener unos vestuarios y la cuestión es que y existe otra cuestión además de cuándo se va a realizar la obra que dice el gobierno

es que de momento la obra está recepcionada por el gobierno vasco pero el ayuntamiento ha dicho que como hay muchas deficiencias y muchos defectos de fallos de seguridad que no se han solucionado pues la obra no la va a ser recepcionada de momento por el ayuntamiento

que los alumnos y alumnas no la pueden utilizar no pueden utilizar la infraestructura yo lo dije el otro día y lo quiero repetir ahora fue la comisión que se creó en el colegio la que fue detectando a medida que iba viendo cómo iban trascurriendo las obras las deficiencias y los fallos de seguridad que se iba viendo

que se iba semanalmente

pues la verdad es que si es así

yendo semanalmente a la obra no se pudo ver los fallos y deficiencias

y no como ahora que lo que hemos lo que ha ocurrido es que

esos fallos y esas deficiencias y ahora hay que pagar a otra empresa para que solucione esos fallos y esas deficiencias en un tiempo extra

durado la obra y una de las preguntas que quiero hacer y aquí paso de lo particular a lo general esto se hace en todas las obras no se ven a tiempo los fallos y deficiencias se recepcionan las obras con los fallos y deficiencias y luego ya nos volvemos a gastar más dinero en lugar de haber solucionado durante mientras estaban haciendo porque no son vicios ocultos

en derecho existe una acción verdad que permite reclamar cuando uno en una obra ve un vicio oculto pero esto de oculto tiene poco

con que tengas dos ojos y vayas allí eres capaz de verlo perfectísimamente una puerta cortante en una infraestructura destinada a niños pequeños que todos sabemos verdad

y efectivamente vamos palabra

y viendo cómo era la puerta lo que tenían que haber hecho es haber cambiado la puerta no la van a cambiar ahora las rampas que cogen una altura importante verdad con unos muros importantes lo mismo a un niño le dice que no te subas al muro eh y el niño vamos

tuvieron que pedir pusieron una red o malla llamase como quiera que si uno se apoya verdad

lo que lo van a utilizar para jugar la malla o la red como cama elástica

fuera red y fuera malla fallos de seguridad

que es que antes de recepcionar la obra se tendrían que haber arreglado

y aquí vuelvo a lo general esto se hace habitualmente las visitas semanales de la obras ejecutadas por el gobierno vasco son de esta entidad tiene que ser una comisión

cómo y decírselo al gobierno vasco porque el gobierno vasco hace un informe sí pero es que el informe lo hace

van a una visita verdad y allí realizan un informe que tiene fecha de quince de enero

y hay que pagar más para resolver estas deficiencias y la cuestión es que el ayuntamiento de bilbao

que hasta que los fallos de seguridad y las deficiencias no estén solucionadas no recepciona la obra y lo que he dicho antes si no recepciona la obra los niños no la pueden utilizar

bien claras cuál es la otra cuestión que antes de septiembre es decir que durante el periodo estival que se pueden realizar perfectamente esas obras se hagan

esta infraestructura puede ser utilizada yo no sé si alguno de ustedes

me lo va a decir yo por si acaso ya me adelanto que este tema es muy puntual

pero existen razones para llevarlo primero como interpelación y ahora

como dije en el momento de la interpelación y como he repetido hoy aquí yo creo que hay cuestiones que trascienden del tema puntual de este colegio que hacen plantearnos si el modo de proceder del gobierno vasco con estas infraestructuras educativas

de cómo funciona el gobierno vasco es lo que hemos visto en esta infraestructura que no se hace una infraestructura completa que no se perciben a tiempo las deficiencias que hay fallos de seguridad y tampoco se perciben que tienen que ser

no pasa nada la obra se recepciona y luego ya nos encargaremos de arreglarlos constando más dinero y más tiempo pero

muy pertinente que esta parlamentaria lo traía aquí para ensuciar la actuación de mejora de un centro público y utilizar un foro para ello

desde luego que sí para ver si las demandas se solucionan ya y se solucionan a tiempo y se establecen plazos y compromisos y por qué traíamos como he dicho la interpelación para hacer las preguntas y luego la moción por qué porque la moción nos permite o sea no divagar en el aire no debatir aquí y que no

si esto lo llevábamos a una comisión nos plantábamos en septiembre

que nosotros décimos que para septiembre ya tiene que estar solucionado

aquí y a tiempo podemos llegar a un acuerdo en el que se establezcan unos plazos que permitan realmente que una obra como digo tan demandada y durante tanto tiempo

esa infraestructura sea completada con lo que a nuestro juicio es absolutamente necesario desde luego

como pista polideportiva también realmente la enmienda que se presentaba por parte de los grupos que apoyan al gobierno me resultaba muy difícil poder llegar a un acuerdo por eso ni se lo planteé porque nosotros queríamos fechas concretas planteamientos concretos y la verdad es que la enmienda lo que se viene es a decir cuestiones muy generales

con el personal del centro y con los padres y madres con la comisión

le doy las gracias a la señora ubera y al señor martínez

que la enmienda sea aprobada también por los grupos que no la han firmado pero sobre todo lo que esperamos es que la moción vaya

que realmente en septiembre los niños y niñas de luis briñas puedan estar en la pista polideportiva muchas gracias

ardura el colegio luis briñas lo ha explicado la señora

es un edificio de especial interés con una protección determinada es un colegio público en una ciudad que tiene una

calidad de las instalaciones de la escuela pública y la de la escuela concertada en la rapidez que se hacen las obras de algunos colegios

y la rapidez y la calidad en la que se hace en otros centros y una vez más la dotación de la escuela pública en bilbao está totalmente mermada con unas obras que se demoran y que encima cuando se hacen se hacen incompletas y se hacen mal

que no se hubiera hecho si no fuera como ya se ha explicado y como hemos tenido la oportunidad de conocer en la comisión de educación del parlamento y también en otras

sin la permanente movilización de aitas de amas y de la comunidad educativa

briñas de la comisión de aterpe que no solo se movilizó sino que presentó alternativas concretas alternativas técnicas en este parlamento y también al gobierno había una necesidad de crear un patio cubierto bueno ahora tenemos una pista polideportiva

conozco perfectamente ese barrio y ese colegio y las características del edificio

de atrás sabemos que la obra no tiene por qué ser fácil

la pista y nos advierten porque fue la comisión aterpe la que nos advierte también a los grupos de la oposición que

sin una cosa tan básica que es lo que decía al principio sin baños y sin

soluciones técnicas y viables a esa ausencia ha habido movilizaciones

propuestas como digo hicimos una proposición no de ley que salió aprobada en la comisión de educación muy sencilla que decía que había que dotar de baños y vestuarios

gobierno pasa del tema pasa olímpicamente de una decisión del parlamento vasco por la mayoría del parlamento vasco se ha pasado del tema no se ha hecho entonces yo reflexiono es un tema muy sencillo son unos baños y unos vestuarios muy sencillo que lo podemos decir que

mucha afección en la vida real de esa comunidad educativa de los niños y de las niñas de los alumnos y de las alumnas de ese centro pero lo mejor de todo es que

y se hace mal quién se da cuenta de nuevo la comisión aterpe del colegio

ni gobierno la comisión aterpe ya lo ha explicado la señora llanos que si el gobierno iba ahí semanalmente también advertido esos daños pero el gobierno aun así recepciona la obra

unos problemas que no sabemos si el gobierno se los va a exigir o no se los va a exigir a la empresa adjudicataria de la por tanto se hace la obra que quiere el gobierno se incumple una decisión del parlamento

chapucera con los problemas que ya han sido indicados

urtean eginda egotea yo creo que es una transacción posibilista como era ya la primera iniciativa que había aprobado este parlamento en la comisión de educación

que como muchas obras de la educación pública son importantes son necesarias y son urgentes porque no solo estamos hablando

de nuevo si hablamos en esos términos un tema baladí eso afecta a la calidad de vida y afecta a la calidad de la educación pública

de una moción que trata según lo que anuncia de resolver las deficiencias que presenta

y que esté finalizada y en condiciones de ser utilizada antes de comienzo de curso ese es el objeto principal de la moción yo no voy a entrar en consideración sobre las motivaciones que llevan a la señora llanos a presentar el hecho es que está aquí

sabemos las complicaciones que han surgido en este proyecto a pesar de que a priori parecía un tema fácil de solventar en junio del año pasado como ha recordado también la señora ubera

en la que nos explicaron las necesidades que tenía el colegio o mejor dicho las infraestructuras de las que carecían llevaban años solicitando un patio cubierto

los niños y niñas estaban a la intemperie meteorológica y quiero recalcar que esa era la petición inicial de la comunidad educativa del colegio luis briñas no una pista polideportiva cubierta sino un patio cubierto

y lo puedo decir y usted lo sabe señora llanos de primera mano una vez aprobado con la comisión aterpe este proyecto es cuando se amplía la petición

de forma razonable yo no lo discuto pero es una novedad que se introdujo después de llegar al acuerdo de la petición de baños y vestuarios para la que entonces empezó a querer llamar y considerar

y que contara con una pasarela cubierta para los niños y niñas del colegio para que no se mojen a la hora de ir o volver de un sitio

y a la que acabo atendiendo el departamento de educación de un patio cubierto a lo que luego fue derivando que fue otra cosa un poco más allá ya era una pista polideportiva cubierta que por lo tanto requiere la instalación

original nos encontramos además con una realidad añadida que es que al ser un edificio protegido no se puede modificar la estructura ni hacer ningún cambio o añadido

a la propia infraestructura incluso usted lo sabe perfectamente señora llanos se llegó a pedir a la comisión de urbanismo del ayuntamiento que levantase parcialmente la protección

debido a que no se pudo levantar la protección y había que tener un exquisito cuidado en no tocar

y por lo tanto se agravaba también el coste de la petición el colegio es muy simbólico para el barrio no solo porque es el referente de la escuela pública en santutxu sino porque arquitectónicamente supone como referente

hay que reconocer es verdad que sí la obra salió adelante fue por el impulso que se le dio

no fue una iniciativa propia del departamento en el dos mil catorce comenzaron las reuniones del consejo escolar y del gobierno vasco para tratar este proyecto y en el proyecto no se contemplaba los baños ni los vestuarios ni tampoco para la cubierta y en esas primeras reuniones tampoco se expresó ningún rechazo por parte de los representantes del colegio al proyecto que se les presentó como así reconocieron ellos en la comparecencia de la comisión la obra comienza en el dos mil dieciséis y a principios del dos mil diecisiete

en abril se retoma la reivindicación de la construcción de baños

y el problema entonces es el mismo que tenemos ahora esa petición de construcción de vestuarios conllevaba una modificación esta sí sustancial del proyecto constructivo

hubiera tenido un retraso enorme en las obras hasta que se hubiera hecho una modificación

y se hubiera puesto en marcha de nuevo el procedimiento administrativo de adjudicación pero esta construcción de baños y vestuarios con su pasarela cubierta sigue estando

y a pesar de que sea como lo es un edificio arquitectónicamente especial y con un altísimo grado de protección es necesario seguimos entendiendo nosotros rebajar ese indicie de protección y por lo tanto seguimos mirando también

para rebajar ese índice de protección para qué para poder hacer obras que con esa modificación puedan garantizar mejor la seguridad accesibilidad y calidad de los espacios

además de la comparecencia en comisión por parte de la comisión aterpe el grupo de elkarrekin podemos y bildu presentaron una proposición no de ley que se debatió en la comisión de educación de dieciséis de octubre

de la pista polideportiva cubierta del centro luis briñas de baños y vestuarios nosotros ya advertimos como grupo socialista en esa comisión que nosotros coincidíamos con ellos y así se lo hicimos saber previamente a la reunión y después e incluso nosotros entendíamos que la obra de los baños podía ser sencilla de ejecutar

nada más pero que era mucho más complicado en estos momentos ejecutar los vestuarios y hoy es verdad que nos encontramos prácticamente en las mismas circunstancias que entonces

los baños y lo dijimos y estábamos de acuerdo con ello junto con la pasarela cubierta para acceder pero es cierto que nos parecía muy mucho más complicado ejecutar el tema de los vestuarios por lo que podía suponer de retrasos de bastante tiempo en la ejecución

porque por cierto por parte de los técnicos del propio departamento ya se advirtió que eso requeriría una paralización inmediata del proyecto porque incluía una modificación sustancial de todo eso tiene conocimiento la comisión aterpe del colegio por el gobierno vasco

y por otros responsables políticos pero lo que aquí debiera de primar es el uso del edificio como uso escolar para alumnos y alumnas y que puedan tener las mejores condiciones es verdad que la casuística como decía la señora ubera tiene razón de la climatología del país no es solo para el colegio luis briñas es lo que da

porque este verano lleva trazas y por lo tanto habría que tener en cuenta a la hora de prever acondicionamiento de patios escolares tener previsto ya

próximas líneas de actuación de equipamientos de patios que es una de las peleas que hemos mantenido desde las administraciones locales

algún tipo de cubierta pero en cualquier caso centrado sobre todo en el uso escolar del edificio y se deben corregir es verdad todas las deficiencias que tiene este proyecto y que de esta obra se han derivado de acuerdo con la comunidad escolar y con el ayuntamiento de bilbao

con los representantes del centro pero desde el momento en que con esta instalación se pretende dar un servicio no solo al colegio sino también al barrio

empieza a tener ya derivadas hacia el propio ayuntamiento de bilbao

escolar pero en cualquier caso eso es otro debate

antes de que comience el curso escolar en septiembre coincidimos con ustedes para que los niños y niñas puedan darle

y así lo décimos y en la enmienda de totalidad pedimos al departamento de educación que implemente las medidas adicionales acordadas ya

de febrero de este mismo año de manera que estén finalizadas antes del inicio escolar

es este aspecto me tendrá que reconocer que de inconcreciones nada hay una fecha

que es lo que ya se ha acordado con la comunidad educativa y además

de baños y vestuarios en el entorno del patio cubierto por qué

estamos hablando de dinero público y para poder hacer esa

suficiente y eso se hace mediante un estudio de viabilidad económica yo podía discutir el plazo de duración para la confección

que no necesitaría de los seis meses para hacerlo pero en cualquier caso hay que hacerlo salvo que usted me quiera decir que el gobierno vasco adjudique recursos sin tener si quiera constancia de que tiene consignación presupuestaria para hacerlo y por último le instamos al gobierno vasco a que siga invirtiendo en infraestructura educativas porque este problema por suerte o por desgracia se nos va a reproducir en otros colegios de la red pública

y que esas inversiones se hagan en función de las necesidades detectadas y las prioridades establecidas en el plan de infraestructuras dando respuesta a nuevas realidades

en este país para que eso redunde en la calidad del sistema educativo público muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak

egun euritsuetan jolaslekuan jolastu ahal izateko zeuzkaten arazoei irtenbide bat aurkitzea a finales del dos mil trece el equipo directivo del

y la necesidad de crearlos el consejo escolar les trasladó que era una reivindicación de más de diez años

incluyó esta actuación en el plan de infraestructuras escolares

plan de infraestructuras que compone del orden de cerca de doscientos actuaciones

se han sumado otras cincuenta y uno de ahí vemos la flexibilidad

necesidades a solventar paralelamente el partido popular presentó una iniciativa en el ayuntamiento de bilbao requiriendo al gobierno vasco que pusiese una cubierta en el patio presentó una enmienda a los presupuestos del gobierno vasco del dos mil catorce para que la cubierta del patio de luis briñas se considerase una inversión

tanto es así que en la partida de actuaciones de centros escolares se aumentó la partida con un texto expreso sobre la inclusión

donde se pedía el estudio de la instalación de un aterpe o cubierta aldi berean bilboko udal bilkurak ere gaia aztertu zuen

lurzoruak ematea el colegio luis briñas se encuentra ubicado en el barrio bilbaíno de santutxu por lo tanto en un

se trata de un centro escolar situado entre calles y la haurreskola municipal el hecho de que el recinto escolar se encuentre en un espacio totalmente colmatado

konponbideak a la vista de los condicionantes previos existentes y tras el oportuno análisis y contraste técnico

propuso la ejecución de la pista de juegos de forma semisoterrada es decir la ejecución con dos cuerpos diferenciados dentro del mismo volumen el área del espacio cubierto y el núcleo de comunicaciones para poder iniciar la redacción del proyecto de ejecución el ayuntamiento de bilbao dio los pasos requeridos para la disposición de ese terreno anexo necesario se tramitó un estudio

de la actuación en la comisión de patrimonio del ayuntamiento de bilbao

por lo tanto estamos ante un edificio con una protección de nivel b un entorno circundante totalmente colmatado y edificaciones contiguas condicionantes de la solución

de forma muy positiva estamos hablando de una solución constructiva que supone un patio nuevo cubierto de seiscientos metros cuadrados en la parte baja adicionalmente en la cubierta superior el centro gana un espacio añadido de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados que se suman a

no podrán negar que se ha diseñado y dado una buena solución pese a todas las dificultades

ateratzeko para sacar estos baños se proponía aumentar el desnivel de la rampa con lo que no se cumpliría la normativa de accesibilidad joan den ekainean

una cancha en el suelo desde entonces hay quien ha pasado a llamar a ese espacio pista polideportiva generando en la comunidad educativa no sé qué expectativas y comenzando a solicitar los mismos servicios que en el caso de un polideportivo he oído mencionar la palabra deficiencias unas cuantas veces en las

que me han precedido de hecho está en la moción presentada por la señora llanos resulta que consideran deficiencias el hecho de haber ejecutado el proyecto en su integridad el proyecto no se hizo en previsión de crear una pista polideportiva sino un espacio cubierto un aterpe

y como se nos recordó en la comisión de octubre donde debatimos sobre este tema se fueron admitiendo cambios hasta llegar al convencimiento por parte de todos

se le pueda dar un uso social y que nos encontramos con que han ido creciendo las expectativas de posibilidades de este espacio

que cuando se reunió la comisión aterpe con el departamento para tratar de la cubrición del patio no se mencionó nada de baños vestuarios

que para adicionar prestaciones complementarias

habría que realizar una modificación del proyecto original y comenzar su tramitación de nuevo esto dilataría la ejecución

todas ellas cuestiones que no estaban contempladas en el proyecto que la comunidad educativa conocía desde el inicio del mismo

jarraitu dezala y les puedo asegurar que el departamento asumió el compromiso de estudiar las diferentes alternativas para incluir esas nueva dotaciones en el nuevo patio cubierto

y entiendo que intentarán buscar una solución técnica viable dada los condicionante arquitectónicos y de protección cultural del edificio

señora betolaza una tiene imaginación

pero yo le aseguro que hay cuestiones que yo he dicho que no me las he imaginado ni me las he inventado usted hablaba todo el rato de patio cubierto efectivamente los padres y madres del colegio y

principio lo que pedían era la cobertura del patio cobertura del patio exterior es decir tú salías del colegio había un patio exterior y lo que pedían era que ese patio fuera cubierto para que en caso de lluvia

patio que está a la misma cota que el colegio al lado de los baños ninguna necesidad patio

como hay dificultades porque es un edificio que está protegido no se puede hacer ese cubrimiento del patio y entonces se les plantea

a mencionar por parte del departamento que es una pista cubierta y se lo he dicho pista cubierta si tan claro es obra del patio cubierto no no pista

cómo somos en el gobierno vasco que lejos de haceros solo un patio os vamos a hacer una pista cubierta

tiene como finalidad establecer las pautas para construir una pista

y con relación a las líneas no es que las hayan pintado porque una vez hecho ya

que no que está aquí en el proyecto en el proyecto que no es un patio en el proyecto ya están las líneas dibujadas y previstas poner las canastas qué ocurre que evidentemente al principio no pedían los baños porque los tenían al lado cuando ven

a qué distancia tienen que bajar es cuando

a pedir y cuando se les dice que se les han hecho un espacio deportivo cubierto evidentemente un espacio deportivo tiene

suele llevar unos vestuarios y usted me habla de la viabilidad y el señor pastor a quien desde luego le agradezco el tono y algunas de las cuestiones que él ha dicho tiene razón

no se quiso hacer también se pidió un paso cubierto tampoco se ha hecho tampoco se ha hecho porque como el edificio

está sujeto a protección y como ha dicho el señor pastor a pesar de que se ha solicitado al ayuntamiento de bilbao que se reduzca ese nivel de protección no se quiere reducir

que ya están diciendo que por lo menos les permita el paso por el gimnasio para que los niños no se mojen desde que van al colegio hasta que lleguen al patio

lo que en un principio ellos pedían era una cosa que no necesitaba

las deficiencias no son que falten

las deficiencias son otras las deficiencias son otras que no tienen nada que ver con la inexistencia de baños y vestuarios y dice

tal cual el proyecto es decir que estaba previsto en el proyecto que esos muretes sean escalables por niños porque se sabía cuando se hacía a quién iba dirigido

poner unas puertas que cuando pases la mano te cortas que se corta un adulto es decir yo no las toqué

y si llego a pasar más rápido la mano si llego a hacer lo que suelen hacer los niños me corto se lo aseguro que me corto porque con solo hacer así con solo tocar así

ya hay peligro de corte y eso estaba previsto desde el principio pues entonces muy mal

infraestructura y en cualquier caso si estaba previsto desde el principio

que el ayuntamiento de bilbao recepcione la obra porque el ayuntamiento de bilbao lo de los baños y los vestuarios no le impide recepcionar la obra le impide las deficiencias y

puntual que nosotros hemos traído con un objeto muy concreto

el último de una serie de iniciativas que aquí se han traído y que esperamos que estas

como decía la señora ubera se puede sacar

visión general de que por lo menos estas cuestiones que han sucedido aquí

que no es una buena utilización de los recursos públicos porque ahora nos vamos a gastar dinero en resolver unas deficiencias que tenía que haber hecho la empresa

que no se vigiló por lo menos a nuestro juicio suficientemente por parte del gobierno vasco que no se tiene una previsión correcta de los patios cubierto como todos hemos hecho aquí en una tierra que precisamente euskadi tropical no es o sea porque llueve un día sí y al siguiente también

amaitzen joan sí voy terminando señora presidenta yo creo que

debe de servir de ejemplo esta cuestión para que no vuelva a suceder en otros centros públicos y esperemos que en este caso concreto las deficiencias sean corregidas antes de septiembre en septiembre lo puedan utilizar y que desde luego una viabilidad que pueda hacer el departamento en poquito tiempo bueno pues que no sea buckingham palace
que lo haga rápido y se acometa al proyecto pronto gracias eskerrik asko

que se va a hacer un estudio de viabilidad en seis meses a ver si van a poder poner los baños y vestuarios y luego encima tenemos que

no sé a cuantas manos el plan de infraestructuras del gobierno con todos los incumplimientos que sabemos que se están haciendo pues mira hoy tampoco me he levantado con ganas de hacer ese tipo de

entre los grupos de la oposición bastante posibilista con puntos que creo que se pueden

legislación que sabemos que se necesita para poder licitar proyectos y hacer

una obra pública en condiciones lo que no se ha hecho por lo menos hasta ahora

lo que ha dicho el señor pastor que todo el tema de la rebaja del nivel de protección del edificio es así lo que no sé

con sus palabras que sé que no es un departamento de su partido por eso también me preocupa más tenemos que esperar a esa rebaja o el estudio de viabilidad que se va a hacer el seis meses según la enmienda que propone pnv y psoe va a determinar

no se van a hacer o se van a dejar de hacer evidentemente ahora tenemos un equipamiento que puede ser utilizado por el barrio de santutxu además que lo necesita como todos los barrios

dotados creo que el gobierno que hay en lakua y el gobierno que hay en bilbao es el mismo creo que ponerse de acuerdo en una obra que tampoco es tan grande creo que sería bastante

creo que además cuentan con un aparato de propaganda bastante adecuado y grande como para poder vender antes de unas elecciones municipales

la comunidad educativa no por la oposición sino por la comunidad educativa de briñas con la comisión de aterpe creo que lo podrían vender o sea que incluso lo miraría por su parte en cumplir como una oportunidad y señora

diez años para recepcionar una obra mal hecha creo que son bastantes

bastantes cuantos años llevan esperando en san adrián a las obra prometidas en ese plan y en el anterior

gorria en el anterior y en este o cómo se ha hecho cómo se ha ejecutado la obra en miribilla los condicionantes los conocemos señora

lo que se ha construido también lo conocemos lo que se ha hecho mal también lo conocemos lo que se tarda en hacer determinadas cosas en este país también lo conocemos

movilizarse la sociedad vasca para conseguir determinadas cosas también lo conocemos besteak aitzakiak

también aquí en nuestro país necesita de infraestructuras de calidad tiene profesionales de calidad tiene familias implicadas tiene respaldo

nos ocupa hoy que nos ha ocupado días y días en este parlamento que creo que es como para hacérselo mirar por parte del gobierno que esto haya venido

al parlamento creo que es uno de los elementos que puede ayudar a creernos el supuesto compromiso que tiene el gobierno vasco con la educación

acuerdos por algo será por algo será que

escaldados ya de los incumplimientos de este gobierno yo creo que es necesario que además a mí no me gustaría ni siquiera reconozco que el trabajo ha sido mío hablo de mi grupo ha sido de la comisión

que se haga y yo creo que la inmensa mayoría de los grupos

estamos comprometidos con la educación pública y creo que la manera de demostrarlo son con estas cosas que parecen pequeñas pero que en realidad están definiendo el futuro de nuestro país eskerrik asko

nosotros no le venimos aquí a pedir a nadie que aplauda aparte de la base que tenga usted ganas

ni de silbar pero aquí hay un problema de origen que no me gustaría que se soslayase porque se soslaya que es la protección arquitectónica del edificio porque sin esa protección la obra hubiera sido más sencilla más barata y más ajustada a la petición de la comunidad educativa

y no por decisión política en este caso el ayuntamiento de bilbao sino de los servicios técnicos de urbanismo del ayuntamiento que no vieron ni la necesidad ni la oportunidad de levantar dicha protección porque si no

de que lo que ellos pedían era un patio exterior cubierto pensando porque lo detallaron incluso en planos que se podían modificar las ventanas del edificio y eso dio lugar a una cubrición adecuada cosa que no se pudo hacer

de subsanación de deficiencias en la enmienda se utiliza otro termino pero estamos hablando de lo mismo estamos hablando de que probablemente determinados aspectos de terminación de la obra no tiene la adecuada calidad técnica en su terminación

a subsanarlo antes de que comience el próximo curso por lo tanto no hay imprecisión y el otro tema perdona que le diga señor martínez es poco posibilista aunque a usted le parezca lo contrario

de plazo máximo con seis meses porque se sabe ya en qué situación está el edificio pero también hay que hacer un estudio económico y la consignación presupuestaria

cueste lo que cueste eso no funciona así en la administración pública ni en ningún otro orden de la vida

pero eso se puede hacer en un plazo más corto con toda seguridad por lo tanto a pesar de que aquí se dramatiza mucho en el discurso no están tan alejadas las posiciones se trata básicamente

deficiencias que pueden ser subsanables y así se ha pactado con la comunidad educativa y de que se estudie la posibilidad de incorporar por lo menos una de las dos peticiones de la comunidad educativa que nosotros hemos defendido desde el principio que son y que entiendo que es mucho más sencillo de ejecutar que lo que luego se puso encima de la mesa y que la propia comunidad educativa reconoció en la comisión que era mucho más complicado

al plan de diseño de infraestructuras educativas de los próximos años que lo que se haga sobre todo en el exterior se adapte

que la boina no se lleva solo porque quede bonito sino porque llueve eskerrik asko pastor jauna

ez dago gehiago esateko como habrán podido comprobar en mi primera intervención

sobre una pista polideportiva sino sobre un patio cubierto porque tenemos que recordar una vez más que lo que se solicitaba era un aterpe como indica el nombre de la comisión creada para

como dicen esta reclamación viene de lejos pero hay algo que debe de quedar claro ha sido un departamento de educación

quien ha priorizado la construcción de la cubierta del colegio luis briñas frente a otra solicitudes

entre el patio inferior y superior por cierto rampas que tienen un grado de inclinación del dos por ciento totalmente acorde a normativa

a la cual hacían el planteamiento de aumentar esta inclinación de rampa hasta un ocho por ciento para poder incluir los baños en ese espacio pero me pregunto yo

de la rampa y se planteaba como solución aumentar esa inclinación de rampa

los baños yo creo sinceramente que debemos de dejar trabajar a los técnicos a las personas que saben de esta materia

y acorde con el cumplimiento de las normativas a cumplir en las actuaciones en centros escolares

de deficiencias en la realización del proyecto pues no el arquitecto

bien realizada en cuanto a proyecto y cumplimiento de normativas no es el ayuntamiento de bilbao

sino pasar una vez del gobierno recepcionarla mantenerla

y dedicarse a la limpieza y mantenimiento posterior las deficiencias a las que se alude

suscrito por los propios técnicos del departamento con fecha quince de enero sobre pequeños remates que hay que

terminar en obra y que son los mismos que han dado el visto bueno

por tanto dónde están las deficiencias de las que hablamos en todas las obras quedan remates de fin de obra lo que se está aquí erróneamente llamando deficiencias y he de decirles que ante las quejas realizadas señora llanos

pleno de control yo misma he realizado una visita al centro para comprobar

y he podido comprobar que se están realizando medidas adicionales a petición del centro en cuanto a incrementar las medidas de seguridad que ya fueron enumeradas por la señora consejera en la interpelación

medidas adicionales para incrementar la seguridad de los escolares la normativa se cumplía en todo

que hay que cumplirla la cumplía el proyecto estamos hablando de medidas adicionales que se están incorporando a petición

y viendo que estamos hablando de un centro escolar he transitado la rampa desde la cubierta hasta el patio exterior a ritmo de un niño y se tardan dos minutos máximos qué era lo que nos decía

porque nos cargábamos el recreo en el tránsito

acordes a normativas y realizados según proyecto de ejecución pero aun así y todo

de seguridad con las soluciones que aquí se nos explicaron por parte de la señora consejera vuelvo a repetir no es de recibo en lo que es un proceso normal en cualquier fin de obra de eso algo me ha tocado saber estos últimos anteriores

convertirlo en un altavoz y en una constante alarma

por ciento frente al sesenta y tres coma setenta del mismo periodo del año anterior sin embargo en el estado

esta tasa ha caído del sesenta y uno coma veintitrés al cincuenta y tres coma dos

aproximadamente a esos seis puntos gauzak zuzendu ezean

aspecto y es que la menor tasa de desempleo también hace más difícil reducir la cifra de los que llevan más tiempo buscando empleo porque en su mayoría son situaciones que casi se pueden considerar estructurales y que tienen muchas dificultades o dificultades

sara de la rica insistía en la presentación del informe en lanzar una vez más un mensaje a las instituciones y a los organismos competentes o se hacen políticas activas a la carta o las personas paradas de larga duración serán

esta situación nosotras no estamos dispuestas a aceptar que esto sea así y diría por el acuerdo al que hemos llegado que ustedes tampoco

pues le preocupa y les ocupa yo tampoco lo pongo en duda la verdad es que creo

es una preocupación de todas lanerako

orokorregiak eta zehaztasun gabeak zirela afortunadamente el acuerdo alcanzado en esta cámara el pasado mes de mayo en relación a la estrategia de empleo

bueno de alguna manera corrige este planteamiento y plantea definir estrategias y objetivos diferenciados para cada colectivo identificado como vulnerable y eso

hayan podido hacer con respecto a las personas paradas de larga duración

en ese bloque grueso de personas en situación más vulnerable en ese conjunto

del paro de larga duración el paro de larga duración no responde a las medidas generales contra el desempleo

no son eficaces y no siempre se ajustan a la realidad y a las necesidades de las personas paradas de larga duración lo pregunté la vez anterior no obtuve respuesta pero si alguien me puede explicar por qué por ejemplo las contrataciones de los planes comarcales

ocho doce o no podrían estar ajustadas por ejemplo a los años que le puedan quedar a una persona para jubilarse

sus necesidades y lo que se les ofrece como actuación la realidad es que da la sensación de que se actúa un poco por inercias con estrategias que los datos ya demuestran que no son eficaces con medidas que no están suficientemente evaluadas y contrastadas aunque los grupos que sostienen al gobierno

en el anterior debate nosotros consideramos que no se hacen esos itinerarios personalizados que no hay un personal técnico especializado en lanbide especialista que pueda

para que los orientadores puedan hacer sus intervenciones como debieran que no están formados para abordar la parte emocional que

se mencionaba también a las empresas de inserción en aquel debate y es verdad que es una estrategia muy importante pero esta semana también hemos visto cuáles son las fuerzas que este gobierno tiene o que pone en todo el tema del desarrollo de la economía social y transformadora con lo cual ahí también tenemos dificultades para nosotros la necesidad de un cambio de estrategia es ya innegable y palmaria es necesario poner en marcha medidas adicionales

diferenciadas para los parados y paradas de larga duración como nos dicen los expertos como recomienda la comisión europea como un poco nos demuestra la experiencia que estamos teniendo en nuestras actuaciones consideramos que estamos ante una situación excepcional prioritaria diferenciada que requiere también

responde a esa excepcionalidad a esa diferencialidad que tienen estas situaciones y por eso presentábamos hoy

que es un poco la iniciativa que nosotros en la anterior ocasión habíamos transado con elkarrekin podemos

lo que plantea es una estrategia ad hoc una estrategia diseñada específicamente para responder a estas situaciones que están viviendo las personas

orientación formación específica itinerarios personalizados y sobre todo recoge la necesidad de implementar nuevas actuaciones de experimentar con nuevas actuaciones y además adaptar las circunstancias y aumentar los recursos las partidas económicas que se puedan destinar a ello no y además planteamos que

que hay que hacer en este sentido en esa estrategia ad hoc que tenemos que incorporar a los planes anuales que se vayan a desarrollar a partir de ahora en el marco de la estrategia

en ese trabajo como en el seguimiento como en la monitorización agentes sociales que puedan hacer esa tarea de asesoramiento y de acompañamiento y

tras la primera discusión con este tema que tampoco era nueva porque ya venía

saliera adelante hoy estamos muy contentas porque efectivamente nuevamente la mayoría de esta cámara se suma a esta necesidad y de alguna forma

que se ha realizado en otros sitios como nafarroa se aúnan fuerzas para plantear una estrategia que tenga ese efecto de choque que pueda realmente responder a las necesidades que se plantean a estas personas a sus experiencias de vida y creo que es realmente positivo que llegados a este punto hayamos sido capaces de acordar acordar esa dirección acordar también la especificidad acordar ese abanico amplio de acciones y

una realidad que la realidad grave que tenemos en nuestra comunidad de las y los desempleados de larga duración que creo que reconocemos todos los grupos o así al menos quedó patente en el debate de noviembre que tuvimos en esta cámara

sobre esta cuestión y por lo tanto pues desde nuestro grupo nos parece interesante que se vuelva a traer esta cuestión a debate

acordamos entre las coaliciones eh bildu y elkarrekin podemos y que en aquella ocasión

parece ser que ha habido una posibilidad de acercamiento entre los diferentes grupos y que con algunos cambios menores sí que van a ser aprobadas y por lo tanto nosotros

nos alegramos de esto la iniciativa que presentaba eh bildu como ya ha explicado la señora

era la transacción a la que habíamos llegado las dos coaliciones de izquierdas de la cámara noviembre y por lo tanto nosotros no solo es que estemos de acuerdo con ella sino que no hubiéramos tenido ningún problema en votarla a favor y de hecho si no hubiera habido ningún tipo de acuerdo la hubiéramos votado a favor pero nosotros decidimos registrar una enmienda a la totalidad que no era más que prácticamente volver a registrar nuestra enmienda

transacción no se recogieron aunque sabíamos que no había posibilidades

de explicarlos brevemente y también porque esto nos permitía estar en las negociaciones

de las diferentes iniciativas y por lo tanto conocer de primera mano lo que se iba acordando si finalmente

finalmente ha pasado yo brevemente voy a recordar los dos elementos

y que no están recogidos en la transacción uno es volver a insistir

en nuestra opinión de la necesidad de volver a la indexación de la renta de garantía de ingresos al salario mínimo interprofesional

ad hoc en el momento que el salario mínimo interprofesional subía un ocho por ciento y sabemos que esta renta

desempleadas de larga duración y por lo tanto nos parece que esta cuestión tiene que ver con esto de lo que estamos hablando y

también considerábamos oportuno hablar de las prestaciones por desempleo aunque sea una cuestión que corresponde a otras

dugu nosotros tenemos confianza esperamos en que el nuevo gobierno

pueda abordar también estas cuestiones y las aborde sabíamos que estas dos cuestiones a las que me he referido no tenían ninguna posibilidad hoy de ser transaccionadas entendemos que el tema de la rgi

no estaría de acuerdo y por supuesto los partidos que sustentan al gobierno no estarían de acuerdo y por lo tanto esto dificultaría que la iniciativa saliera adelante

ya se dijo en la otra ocasión que se consideraba que no tenía tanto que ver con lo que debatíamos hoy aquí nosotros pensamos que sí pensábamos que es también una buena oportunidad cuando interpelamos al gobierno vasco sobre esta cuestión aprovechar

recortadas en los últimos años y de una manera bastante potente en cuanto a la iniciativa que finalmente se aprueba bueno nosotros pensamos que recoge lo que veníamos proponiendo en la mayoría

a mi grupo desde luego esto nos vale

y se recogen todos los elementos que nos parecen importantes atención individualizada sabemos que se

nosotros pensamos que no existe la señora kortajarena yo comparto lo que ha dicho de por qué algunos grupos pensamos que no existe pero la verdad es que

gobierno vasco ha reconocido que no existe cuando en la reforma que plantea sobre lanbide uno de los argumentos que nos da para intentar convencernos de la famosa polivalencia con la que no están de acuerdo ni los sindicatos ni nosotros pues es precisamente que hay que

individualización de la atención y por lo tanto eso no se hace y creo que el gobierno lo reconoce más allá

cuestiones nos parece importante que los grupos que sostienen al gobierno puedan incluir esta cuestión en una iniciativa transaccionada con nosotros

de las cláusulas sociales nosotros lo venimos diciendo muchas veces sobre esta cuestión y otras nos parece que la administración pública es una herramienta o puede ser una herramienta si lo decidimos así precisamente para facilitar que

más vulnerables puedan tener acceso a puestos de trabajo porque tienen mayores dificultades para acceder a los mismos administrazioaz baliatu behar gara klausula sozialak

con el lenguaje que a nosotros nos hubiera parecido oportuno para hacerlo más contundente sí que se recoge en la iniciativa y nos parece importante luego una cuestión que nosotros incluíamos en nuestra original de noviembre que fue también recogida en la transacción con eh bildu la cuestión de incluir criterios de acreditación para la experiencia laboral yo ya expliqué también la importancia que nosotros le dábamos a esta

ocasión yo me veo muy reflejado en esto yo cuando empecé a trabajar de carretillero no se exigía ningún tipo de título para esto y

que le enseñaban yo el día que tenga que volver a buscar trabajo en un almacén de transporte seguramente me exigirán un título sobre el manejo de una maquina que sé manejar perfectamente

esto se adecúe y las personas que tienen experiencia tengan otro tipo de tratamiento a la hora de acreditar conocimientos y finalmente también

de los diferentes agentes que tienen que opinar sobre estas cuestiones

mucho hincapié en el tema de los sindicatos pero también el resto de agentes pero es verdad que esto aunque hoy se firma nosotros entendemos ya lo he explicado en otras ocasiones que ahora mismo el gobierno lo tiene complicado para llevar a la práctica esto

firmado con confebask del que ya hemos discutido va a dificultar precisamente que se aborden estas cuestiones de la manera en la que en esta transacción se dice porque ese acuerdo

habla precisamente de la formación etcétera por lo tanto veremos cómo resuelve esa patata caliente el gobierno que tiene sobre la mesa y que ha generado él solito y finalmente se incluye nosotros pensamos también que es muy importante el papel que tiene que jugar lanbide en todo esto nosotros pensamos

también a la hora de las relaciones a la hora de plantear la cuestión de las desempleadas y desempleados de larga duración y por lo tanto a nosotros nos parece que finalmente la transacción es buena

en la posición de los grupos que sostienen al gobierno respecto al debate que tuvimos en noviembre porque era prácticamente las mismas medidas nosotros la verdad nos alegramos de esto y sobre todo nos alegraremos cuando estas medidas puedan tener

y poder paliar la situación que es grave o muy grave de ya se ha explicado de las y los desempleados de larga duración que tienen unos números importantes en

egun on guztioi debatimos nuevamente una proposición no de ley a iniciativa de eh bildu sobre medidas necesarias para atender adecuadamente a las personas desempleadas de larga duración una iniciativa que es idéntica como ustedes muy bien han dicho la que se sustanció ya en este pleno el pasado año en noviembre y que a pesar de constatar entonces todos los grupos parlamentarios que se compartía una preocupación por la situación de este colectivo de personas

de llegar a un acuerdo yo no voy a entrar en análisis de por qué o cuáles fueron las razones para que no lográramos en aquel momento ese acuerdo eso lo voy a dejar

yo he tirado de hemeroteca y creo que queda claro también que no hubo igual el suficiente esfuerzo lo cierto es que hoy tenemos una nueva oportunidad que hoy hemos sido capaces

un consenso y que eso ciertamente como han dicho el resto de portavoces que me han precedido pues es

han transcurrido meses y meses desde aquel debate y el tiempo

repetimos en debate el gobierno ha estado además de preocupado ocupado en este asunto y lo digo y la señora kortajarena me dirá

el gobierno ha estado preocupado y ocupado en este colectivo y se ha ido avanzando en la adopción de acuerdos en esta materia todos ustedes saben que en aquel tiempo no teníamos pero ahora sí que contamos con un plan estratégico de empleo dos mil diecisiete

sobre el que tuvimos la oportunidad de debatir y de acordar aquí el pasado mes de mayo un acuerdo

de toda la cámara algo que también pudiera repetirse hoy con respecto a este colectivo un plan estratégico

combina por un lado un punto de vista estratégico cualitativo y por otro lado medidas para la consecución de objetivos que están marcados para la generación de empleo y un empleo que tiene que ser de calidad es un plan que recoge objetivos vinculados a la mejora de calidad del empleo en respuesta por un lado a esa detección del riesgo de la temporalidad y la parcialidad no deseada y que luego tendremos oportunidad de hablar desde otro enfoque

que presentan un menor grado de empleabilidad y para ello ese plan estratégico señala líneas concretas de actuación muy similares no nos engañemos

de la atención individualizada a las personas desempleadas a través de lanbide

como herramienta de trabajo a los planes de empleo a los incentivos a la contratación y a la acreditación de conocimientos por experiencia laboral de todo esto tenemos referencias en el plan estratégico por tanto señora kortajarena no estamos tan desalineados ni errados de rumbo

podíamos compartir este planteamiento que se realizaba sobre las actuaciones que ustedes nos proponían

puntos la verdad es que creo que pocas sorpresas se pueden esconder en la posición que los socialistas y los nacionalistas podemos tener en esta materia se lo digo porque nosotros pusimos negro sobre blanco

a alcanzar el acuerdo de gobierno que suscribimos entre los dos grupos y que da sustento al gobierno vasco en él en aquel documento

en las políticas de lucha contra el desempleo se priorizarán las actuaciones para promover y favorecer la empleabilidad de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de inserción

mujeres y personas dependientes de algunos de estos colectivos ya hemos hablado en alguna proposición no de ley que también hemos sido capaces de pactar en este parlamento y también decíamos en ese documento de pacto de gobierno que se incluirá un plan específico

la inserción los planes de empleo local y comarcal y que se promoverá para todo ello una reforma y modernización de lanbide que refuerce sus funciones de orientación

en búsqueda de empleo a colectivos con mayores dificultades y todo ello basado en itinerarios individualizados de inserción laboral

de la proposición no de ley que ustedes traen a este

de empleo que reconoce literalmente que las expectativas de creación de empleo que existen para que supongan una oportunidad real para aquellas personas que presentan en la actualidad una menor empleabilidad como es el caso del colectivo sobre el cual estamos debatiendo hoy es necesario incidir por un lado en una oferta de incentivos que en mejores condiciones respecto del conjunto de la población desempleada y por otro lado en ofrecerles un servicio de valor

intervención personalizada y bajo el concepto de itinerario individualizado esto lo dice nuestro acuerdo de gobierno con el partido nacionalista lo dice el plan estratégico

de forma expresa se recoge también que se propiciará para estos colectivos de especial vulnerabilidad procesos de capacitación complementaria o de recualificación así como

jon hernández aquí pues preocupa porque lo que antes no exigía

con una acreditación por tanto yo creo que podemos decir sin miedo a equivocarnos que estamos todos en la misma

y que compartimos todos tanto los socialistas como eh bildu como podemos como el grupo nacionalista los mismos mimbres para el desarrollo de las políticas publicas y eficientes para que se pueda dar unas oportunidades reales a este colectivo creo que todos miramos en la misma dirección y por eso fuimos capaces en mayo de cerrar un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de la cámara y yo creo que ese ha sido también el motivo por el que hoy hemos podido también llegar

les hemos ofrecido lo mismo que les ofrecimos el mes pasado no tenemos diferencias de base y ustedes lo saben aunque quieran resaltar algunas y por eso creemos que es factible que hoy podamos llegar a un acuerdo para ampliar algo que ya estaba recogido en el punto cinco del acuerdo de mayo y que hace referencia a esos cinco puntos que les

jon hernández o sea que señalar que cuando uno quiere llegar a consensos si se parte de la misma base si se cuenta con los mismos

alcanzar el mismo realmente lo que estamos pidiendo aquí no son medidas nuevas sino ustedes me las comentan cuales son las nuevas de las que yo le he mencionado que no están y ustedes nos propongan aquí realmente lo que estamos haciendo hicimos también la otra vez es que en los planes de empleo

o se refuercen medidas completas para el colectivo de desempleados de larga

de forma unánime seguramente ratifique este pleno es decir en que creemos que lanbide tiene que hacer con este colectivo una atención individualizada en cuanto a la orientación la formación y la mediación creemos que la colaboración entre distintos organismos públicos y agentes socioeconómicos es el instrumento sobre el que tiene que pivotar

para todas las políticas públicas de empleo que los planes de empleo tienen que estar adaptados a estas personas y preguntaba la señora kortajarena y a mí no me correspondería contestar

ocho algo que no solventa seis igual la cuestión es más si no tendríamos que ser igual más estratégicos también desde las corporaciones locales que son las que tienen que dar el impulso en este tema de planes locales y yo he gestionado en un ayuntamiento y sé lo que significa para tener una programación anual de planes de empleo verdad fase uno fase dos de tal forma que cuando pase

en los ayuntamientos y es cierto que es un esfuerzo compartido que tendrá

en mayo y se lo voy a repetir ahora es posible llegar a un acuerdo porque como ustedes muy bien han dicho y se lo diremos siempre

este tema repetirlo no creo que sea malo ni que sea para echárselo en cara a ninguno de los intervinientes simplemente cuando nos coincidimos en el objetivo

de dejar otras cuestiones en el tintero y conseguir acuerdos que beneficien a quienes realmente
lo necesitan muchísimas gracias eskerrik asko castelo andrea

erantzuna el gobierno como ustedes mismas reconocían y hoy también se ha mencionado está preocupado por este colectivo de personas

porque es cierto que corren el riesgo de cronificarse de que esta situación sostenida en el tiempo haga mella en su autoestima que les deje en una situación

y de hecho el departamento está trabajando con la universidad del país vasco con personas expertas en la materia entre las que se encuentra sara de la rica que también ha sido mencionada hoy y también lo fue el día de la interpelación y con su

más concreto y actualizado de este colectivo en el que se incluyen distintas personas con sus circunstancias particulares por ejemplo dentro de este colectivo

es más baja que la de las mujeres por lo tanto habrá que tomar medidas específicas e individualizadas para cada una de las personas que forman parte de este colectivo

y lo mantenemos hoy no compartimos la necesidad de realizar un plan de choque específico para este colectivo de personas desempleadas de larga duración

sobre los que hemos debatido en otras ocasiones nos parece más acertado contemplar medidas amplias en el plan estratégico de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte que se irán desarrollando anualmente con medidas concretas encaminadas a mejorar la inserción laboral de este colectivo medidas

y los ajustes pertinentes en el caso de que las mediciones así lo recomienden eta funtsean ados gaudenez erdibidekoa sinatu dugu eta

tercero de los puntos que solicita el grupo proponente y que así se recoge en la transaccional

que lo que son necesarias son nuevas medidas recogidas en dichos planes anuales con la finalidad de crear y facilitar oportunidades laborales permanentes e incentivos para la contratación aumentando para ello las partidas económicas asimismo los grupos que sostenemos al gobierno

para contratar a personas desempleadas de larga duración en las contrataciones públicas siempre que la normativa lo permita y así lo hemos plasmado en el punto cuarto

laboral estamos de acuerdo y ya se han dado pasos en este sentido es un tema que lleva tiempo en la agenda de este parlamento

anteriores nos parece necesario como apuntaba el señor hernández en su cuestión

con una experiencia laboral enorme en puestos concretos puedan acreditar sus conocimientos precisamente por la práctica por la experiencia aunque carezcan de una titulación específica y por eso estamos dispuestos a seguir trabajando en este ámbito cosa que se viene haciendo pero estamos dispuestos a profundizar en el mismo

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos

escuchando a los grupos que apoyan el gobierno y teniendo en cuenta bueno por una parte que parece que todo se está haciendo y por otra parte

que en cambio con todas las cuestiones que se planteaban en la iniciativa también se está de acuerdo lo que no sé es cómo no se aprobó por unanimidad y no se hubiera tenido que traer hoy aquí otra vez efectivamente esta iniciativa ya estaba debatida y la verdad es que los argumentos y razones que yo voy a exponer son los mismos que dije en el momento en el que se debatió nosotros no habíamos presentado enmienda porque en su momento ya estábamos de acuerdo con la iniciativa y que se ha vuelto a reiterar y que por lo tanto

que el empleo es el problema que preocupa a todos los ciudadanos el primer problema que preocupa a los ciudadanos a los vascos y también al resto

la mayor preocupación y esa preocupación se agudiza aún más en un colectivo como el colectivo de parados de larga duración porque evidentemente cuanto más se tarda en encontrar empleo pues

se tiene para acceder de nuevo al mercado de trabajo la crisis ha agravado la situación de este colectivo ha producido graves riesgos de cronificación y por tanto de exclusión social en ese momento cuando se debatió esta cuestión teníamos el informe laboral de los primeros trimestres del año dos mil

y es verdad que se señala que la recuperación del empleo ha sido importante en euskadi pero sin embargo dice que la cronicidad del desempleo de larga duración se sigue manteniendo y esa cronicidad se reduce en euskadi mucho más lentamente de lo que se reduce en el resto de españa en los datos de mayo vemos que hay ciento veintidós mil ochocientos uno personas que estaban

se ha reducido en uno coma sesenta y ocho por ciento pero por debajo de la media española

a niveles de desempleo desde diciembre de dos mil ocho en euskadi por territorios el menor descenso se ha producido en álava por debajo de la media de euskadi y además en una cuestión que ya viene siendo pues habitual

más lenta va en cuanto a la recuperación del empleo el número de parados de larga duración

muy elevado más del sesenta por ciento de los desempleados llevan más de un año en situación de desempleo

más difícil como decíamos es esa incorporación del mundo laboral y en este momento

situación con lo cual es necesario actuación y compromiso desde las políticas públicas para encontrar salida a esas personas como se ha mencionado aquí la catedrática de economía sara de la rica en ese informe laboral que como digo ya

lo que viene a decir es que el desempleo de larga duración se está convirtiendo en estructural en euskadi que en el año

pero que sigue euskadi sigue estando a la cabeza en este tipo de desempleo que en la media española he separado yo tengo los últimos datos que no discrepan pero están casi a la par de los

en la media española es un cuarenta y dos coma ocho por ciento luego vemos que la diferencia entre la tasa de desempleo

y la de euskadi cada vez pues esa diferencia se va haciendo más grande y como se ha dicho aquí la señora de la rica decía textualmente

esas causas no que es principalmente como decía

adicionales para la vuelta al mercado laboral de esos empleados

que euskadi cuenta con una población envejecida parados cronificados con grandes dificultades

que no requieran una alta cualificación porque el mayor peso de la industria en euskadi y un tejido productivo más avanzado juega en contra

de estos desempleados el perfil lo daba ella

en el desempleo y por lo tanto nos daba también la solución qué era lo que había que hacer medidas integrales medidas específicas y con formación también especifica luego esto también nos daba una

por donde se tenía que ir en la enmienda en la que se hacía y aquí también se ha hecho referencia en las intervenciones se decía que en el plan estratégico de empleo de dos mil diecisiete dos mil veinte

esos incentivos de la inserción laboral de los colectivos desfavorecidos y en el tres

también están es verdad que aparecen en esos planes como han aparecido en planes y estrategias anteriores quiero decir que tampoco es nuevo el tratamiento

un colectivo que ha preocupado y nosotros no negamos que ha preocupado a los distintos responsables del gobierno vasco pero a lo mejor también

hay determinadas medidas que no acaban de surtir efecto de que la situación

medidas diferentes y así lo señalaba también la comisión europea en su recomendación a los estados miembros en el que aconsejaba implementar medidas

de larga duración de nuevo al mundo laboral medidas

planes personalizados con itinerarios también personalizados con acciones concretas e individualizadas en el plan estratégico de empleo también es verdad

de tratamientos específicos se ha dicho aquí

trabajar a través de las empresas de inserción incentivos a la contratación es verdad

se recogen pero la verdad es que parece que no son suficientes porque los datos las cifras siguen estando ahí

y no conseguimos que descienda al ritmo que desciende el resto del desempleo

pero ese nuevo impulso nos parecía correcto y en ese sentido como digo

nos parece que los puntos que están recogidos en la enmienda de transacción son adecuados en el sentido de que pide también esa actuación conjunta de entre todas las instituciones que todos esfuerzos se aúnen para conseguir este

cada institución no pierda esfuerzos y recursos públicos yendo cada uno por su parte el hecho de que también como ha dicho el señor hernández

para la contratación para dar incentivos a la contratación de estas personas nos parece también pertinente y procedente creemos que a través de las cláusulas sociales que es un instrumento que las instituciones públicas que siempre dentro de la legalidad como decía la señora arregi y que yo estoy de acuerdo pero que a través

utilizar para conseguir la inserción laboral de este colectivo que es más difícil a lo mejor

de la contratación pública y también la cuestión relativa a la acreditación de la experiencia laboral efectivamente es verdad que ahora

muchas empresas en muchas situaciones se exige acreditar se exige una titulación que probablemente la experiencia laboral

es necesaria reflejarla a través de una acreditación de una titulación que es necesario desde las administraciones públicas dar facilidades para que la misma se produzca por eso yo creo que

es una enmienda adecuada es una enmienda pertinente y que lo que esperamos es que realmente se ponga que se cumpla y que el año que viene estemos hablando

mucho menores del paro de larga duración nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea

aclarar que la posibilidad de este acuerdo la hemos ofrecido nosotras y eso es así no ustedes hau ez da

si todo se está haciendo si como nos dice sobre todo la señora castelo todo se está haciendo todo está recogido

en esta dirección yo creo que el gobierno entonces debería reflexionar muy seriamente sobre los resultados que está obteniendo

como ya hemos dicho estamos a la cabeza en lo referente a la tasa de personas paradas de larga duración con lo cual si todo se está haciendo si todo está bien direccionado

cómo ustedes firman una enmienda que viene a completar algo si todo se está haciendo

que hay muchas cosas sobre las que reflexionar creo que hay muchísimas cosas porque nos lo dicen las personas expertas porque nos lo dicen las personas que están viviendo esta situación porque

y porque vemos qué dificultades tiene todos los días lanbide y sus profesionales para salir adelante hay un proceso de modernización de lanbide que habla precisamente de este tipo de cosas usted nos decía que en la estrategia de empleo está ya todo todos estos elementos

dentro de un saco muy grande que es el de la atención a las personas con dificultades

y como ya le he explicado hay realidades muy diferentes situaciones muy diferentes

que tenemos que explorar que tenemos que explorar otras vías para dar una solución a la realidad de las personas paradas de larga duración y eso es lo que nosotros hemos planteado

ad hoc para las personas paradas de larga duración que no estaban recogida como tal como una estrategia ad hoc

en la estrategia dos mil diecisiete dos mil veinte y ni siquiera aparece además como objetivo de esa estrategia aparece como debilidad aparece como un elemento que hay que incorporar pero así como los jóvenes aparecen como objetivo estratégico en esa estrategia las personas para las de larga duración no

pero es esa estrategia de saco la que entendemos

contentas porque el acuerdo alcanzado hoy sumado al que se alcanzó en materia de atención a las personas más jóvenes y ese acuerdo de complementar la estrategia de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte pues con todo ello hemos conseguido complementar

y redefinir unas políticas de empleo que presentaban importantes deficiencias y esto va a permitir que se vaya a ir aterrizando una estrategia de empleo

que tenemos como país que es lo que verdaderamente nos preocupa y todos esos acuerdos que además han sido adoptados por amplias mayorías vienen a marcar

que además entendemos que es la que tiene que ser y es la de utilizar las políticas públicas con liderazgo público para facilitar el buen vivir de las personas

de ser felices de tener posibilidades de vidas dignas y eso es lo que deben facilitar las

más que contentas con este acuerdo y con todo el tránsito del abanico de acuerdo que hemos conseguido

que consideramos que o no se hacen o no se hacen adecuadamente

ese debate sobre si estas medidas son nuevas o no son nuevas nos interesa porque creo que es lo constructivo

continuamente que tenemos un problema y que por lo tanto hay que actuar y parece que coincidimos en las medidas más allá que unos consideren que se están haciendo y otros consideremos que no se están haciendo o que no se están haciendo de forma suficiente

muy interesante si los grupos estamos de acuerdo

y los grupos que sostienen al gobierno consideran que eso ya se está haciendo pero que los resultados no son positivos pues tendremos que hacer una reflexión todos los grupos todos los grupos tendremos que hacer una reflexión de a qué se debe esto

desde el papel y desde la responsabilidad que tiene y más allá de los grupos parlamentarios el gobierno compuesto por partido nacionalista vasco y por partido socialista tendrá que hacer una reflexión al respecto

con que los problemas que tenemos y que no solucionamos respecto a las desempleadas de larga duración igual tienen más que ver con el cómo y no con el qué si estamos de acuerdo en una serie de medidas que son fáciles de recoger incluso en los acuerdos de gobierno quizás tenga que ver más

esas medidas eso como elemento de reflexión yo sí que quería señalar dos cuestiones que me parecen que van a dificultar que acuerdos como este a la práctica y por lo tanto que tienen que ver precisamente con el cómo una de ellas

en el acuerdo al igual que en otros acuerdos a los que hemos llegado se habla de la necesidad de la participación de los agentes

en que ese acuerdo que se ha firmado con confebask de manera unilateral

y va a impedir que estas cuestiones se aborden con los agentes sindicales como se debieran abordar y una segunda cuestión que es la reforma de lanbide si el gobierno insiste en la reforma de lanbide

especialmente con la cuestión de la polivalencia pues seguramente será difícil que la atención individualizada a la que hacemos referencia

se lleve a cabo con buenos resultados por lo tanto quizás no tenga tanto que ver en el qué en qué cuestiones pongamos en el papel

sino sobre todo en el cómo se vayan a llevar a la práctica por lo demás nosotros nos alegramos desde luego del acuerdo y esperemos como decía antes

por la razones o los motivos por las que no llegamos a acuerdo se lo he dicho en mi primera intervención lo dejo para la reflexión de cada uno

que hemos conseguido llegar a un acuerdo porque se ha insistido en esa posibilidad y hay alguna cosa que yo creo que no se está entendiendo es decir desde aquel debate en noviembre y desde aquel informe de sara de la rica que ustedes ya lo utilizaron en el mes de noviembre hay un nuevo documento y es un documento estratégico que lo hace es marcar la dirección ese documento estratégico no dice que se están realizando acciones

y creo que en esa dirección es donde no tenemos tampoco diferencias creemos que en este colectivo en concreto

para complementar a través de los planes anuales que por cierto son los que tienen que dar cumplimiento a ese plan estratégico y veremos

proposiciones no de ley tienen o no tienen sus resultados acuérdense ustedes que el mes pasado también acordamos que a través de la prospectiva y de la evaluación de los resultados de los diferentes programas veremos si tenemos que ir corrigiendo el rumbo pero sí que es cierto que polemizare y lo haré siempre con respecto a que las medidas que hoy se nos ponen encima de la mesa

y a lo que es un poco la dirección que tanto el partido socialista como el partido nacionalista tomaron como base para su acuerdo de gobierno y lo digo y lo digo desde el convencimiento absoluto y ustedes lo tienen ningún documento que se suscribió ya en el dos mil diecisiete y que ustedes tienen una estrategia la señora llanos lo ha dicho

y serán esas acciones concretas donde tendremos luego que ver si los resultados son o no son los que esperamos o los que queremos pero no pasamos o no pasa nada

a la orientación a la formación a la incentivación a la acreditación a los itinerarios individualizados a la cooperación y la coordinación

a los incentivos es que de fuera de todo eso no ha habido ninguna otra medida pero es que tampoco nadie dice que tienen que ser diferentes lo que creemos es que todos estamos orientados en la dirección correcta y eso es lo que yo le intentaba trasladar es decir

hacia dónde tenemos que ir para conseguir que haya oportunidades reales para estos colectivos de especial

los parados de larga duración no solamente están en ese capítulo

o puede ser mujer y parado de larga duración o puede ser joven y parado de larga duración cuidado

bueno por eso el tema de la orientación individualizada yo creo que decían es importante qué hacemos y cómo lo hacemos

y desde la coordinación coordinación interinstitucional porque aquí

son las entidades locales son los ayuntamientos son las agencias locales de desarrollo comarcal y ahí también tiene mucho que ver el éxito

locales y comarcales por tanto voy a también finalizar ya mi punto agradeciendo el esfuerzo por llegar a acuerdos

vamos a dar una opción a que este plan estratégico en sus planes anuales vaya ofreciendo unos resultados

los que esperamos iremos corrigiendo el rumbo de la nave pero la nave sabe perfectamente a dónde tiene que ir

la verdad es que lo decía el señor hernández lo decía la señora kortajarena nosotros no décimos y creo que aquí nadie ha dicho que el gobierno vasco no haya hecho nada

no tenga planificado nada ni que no tenga pensado nada pero evidentemente las cifras están ahí y no somos nosotros son informes de organismos como en este caso

llevar a cabo cuestiones diferentes que hay que tomar medidas distintas porque realmente

de los parados de larga duración hay distintos colectivos también lo ha dicho la señora kortajarena afecta

que a las mujeres de determinada edad entonces claro

en función de la tipología de cada uno de esos grupos de parados de larga duración pero es que señora castelo oyéndola a usted diciendo que todo están en los planes que todo se está haciendo y que todo estaba en el acuerdo de gobierno yo la verdad es que no sé por qué han firmado esta enmienda de transacción no pasa nada no pasa nada

no es necesario nada porque todo se está haciendo bien pero realmente

que eso que ya se estaba haciendo ahora se haga mejor y como he dicho en mi primera intervención dentro de un año

sean muy inferiores y estemos a la cabeza precisamente por la disminución y no por el número de parados de larga duración que tenemos en este momento que es como estamos muchas gracias